buenos días señorías señores consejeros señor lehendakari

del tranvía en vitoria ampliación angulema universidad

sostenible de espacio público hablo de este plan del ayuntamiento de vitoria porque es el argumento que eh bildu utiliza para apoyar esta ampliación del tranvía

porque este proyecto se realizó sin atender a un diagnóstico previo de necesidades de movilidad sin tener en cuenta las infraestructuras existentes del momento

movilidad abandona la idea del tranvía para el eje norte sur y propone autobuses de alta capacidad

ampliación del tranvía donde realmente están las necesidades que es salburua y zabalgana este proyecto carece de participación ciudadana

aretxabaleta que se descarta porque llega el soterramiento

plan de movilidad en el que se acuerda establecer canales de participación para la implantación

en vitoria donde se propone también crear una comisión de transporte público y un foro de participación ciudadana que participen las asociaciones

en este plan se realiza un informe de la realidad y se recoge la incertidumbre del modelo de movilidad dado que llega el ave y no se conocen detalles

para poder gestionar las consecuencias en términos de generación y atracción de nueva movilidad señorías los vecinos de san cristóbal y adurza se oponen a esta infraestructura porque no atiende a su demanda de movilidad porque demandan conexiones con los polígonos industriales porque demandan conexión directa

nuevas consultas de vitoria de la zona de txagorritxu que no les proporciona el tranvía sí les proporciona

porque llegan antes desde las paradas actuales de angulema y parlamento este proyecto no aporta beneficio a los trabajadores de osakidetza que están en el entorno lo único que les afecta es negativamente las más de doscientos plazas de aparcamiento que se van a eliminar proyecto que no reduce el alto volumen de vehículos motorizados que transitan por las calles de san cristóbal y adurza sí reduce de manera sustancial

en dos metros o menos en muchos casos en muchas zonas donde desaparece el arbolado de manera considerable todo esto desnaturaliza las calles y resta calidad al espacio público condenando a los vecinos a más ruido a más calor a más polvo a más inseguridad quiero recordar que uno de los objetivos principales del plan de movilidad del ayuntamiento de vitoria que luego

accesible confortable y segura ampliando los espacios peatonales y reduciendo el espacio dedicado al transporte motorizado para de esta manera mejorar las condiciones de confort acústico y calidad del aire oiga esto decía el plan de movilidad realmente lo que se consigue con la implantación de infraestructura en los barrios de san cristóbal y adurza es todo

tanto en el plan de movilidad como en la ordenanza de tráfico del ayuntamiento de vitoria el ciudadano el peatón es prioritario por delante de todos los demás modos de movilidad las personas este gobierno lo ha repetido hasta la saciedad el señor lehendakari lo ha repetido

las personas la prioridad en esta infraestructura las personas no son la prioridad las personas

unas consecuencias nefastas en su calidad de vida tanto el plan de movilidad sostenible de espacio público de vitoria dos mil ocho como la estrategia de infraestructura verde de vitoria de dos mil catorce

se fomenta la movilidad peatonal ampliando las aceras

de la calidad ambiental de nuestras ciudades y cascos urbanos y en todo este procedimiento no se ha tenido en cuenta el soterramiento de la vía de renfe coinciden plenamente aquí nos remitimos a lo que dice el colegio oficial de arquitectos que ya lo dijimos en la interpelación

al proyecto de soterramiento del ferrocarril madrid irún a su paso por vitoria

entre los barrios actuales desapareciendo puentes y pasadizos

que conecte en línea recta varias zonas de vitoria desde salburua

sin causar efectos negativos señorías yo creo que estos elementos

moción decíamos también en la interpelación que este proyecto debe cumplir la normativa específica en materia de ferrocarriles la ley treinta barra dos mil quince

para recoger la figura del sistema general ferroviario tal y como le obliga la ley hay que dar una solución

porque no admite el ferrocarril como vehículo que puede transitar por las calles esto es imprescindible modificar también varias zonas que se van a ocupar por esta infraestructura

esto se da en diversos puntos del trazado eso que escasamente es

aceras espacios libres espacios verdes nuevo carril bici

inadaptación del planeamiento vigente al trazado aprobado en el entorno del puente de triana en la fuente de la salud en el hospital militar en el del complejo universitario

del dos mil diecisiete se publica el decreto de formulación de la modificación del plan general para establecer y delimitar un sistema general tranviario en el ayuntamiento de vitoria pero es que antes de esto el veinticuatro de abril el gobierno vasco ya resuelve

una modificación del plan general ya estamos iniciando el procedimiento de expropiaciones

sin respetar el plazo anterior euskal trenbidea sarea licita la obra del proyecto constructivo la ampliación del tranvía a la universidad oiga pero qué prisas pero qué pero por qué esta celeridad saltándose los procedimientos solapándose los plazos todo esto sin haber publicado la aprobación del proyecto constructivo entendemos que si no se publica la aprobación del proyecto constructivo no se puede entender producida la declaración de utilidad pública

la necesidad de expropiación y la declaración de urgencia de la misma en el proyecto constructivo se realizan importantes modificaciones respecto al estudio informativo

todo esto al no publicarse se oculta a los ciudadanos dónde está la transparencia cómo han podido hacer alegaciones

no han podido señores de la transparencia esto qué es tanto que les gusta compararse con otras comunidades autónomas les podré decir

de la distancia que hay que respetar según la ley treinta y ocho barra dos mil quince del sector ferroviario establece

estas medidas deben ser respetadas para garantizar el tránsito de peatones también por razones de seguridad de los peatones

o descarrilamientos del tranvía que ya se han producido en vitoria el tranvía no permite el paso de

la catenaria y como les decía tanto que les gusta compararse por ejemplo cataluña tiene ocho metros de servidumbre y veinticinco de zona de afección valencia tiene ocho metros de servidumbre y cincuenta de zona de afección

a menos de cuatro metros de las viviendas entre uno y cuatro metros esto es una auténtica barbaridad no sé si es ilegal

legal o no pero lo que es una invasión del espacio peatonal

que está plenamente invadida podíamos ver la semana pasada muy cerca de aquí cómo por tener que entrar una ambulancia

los tranvías toda la circulación porque no hay acceso señorías la verdad la señora consejera nos decía el otro día

que no le hable del plan de movilidad de la ciudad de vitoria simplemente

la coordinación interinstitucional el plan de movilidad de los cascos urbanos debe estar coordinado con aquellas instituciones que impulsan infraestructuras de movilidad por lo tanto claro que tienen directa relación

con las infraestructuras que impulsa el gobierno vasco y eso tiene que ser fruto de la coordinación porque esos planes de movilidad han sido fruto del acuerdo de toda la representación de la ciudad de vitoria en este caso el plan de movilidad de vitoria

dice es recomendable que sea tratado de manera conjunta ambas actuaciones la ampliación del tranvía y el soterramiento lo dice expresamente y además

sí recoge el tranvía sur el plan de movilidad marca preferencias y urgencias primero

segundo los autobuses de altas prestaciones tercero que se estudie

soterramiento de las vías de renfe por lo tanto eso es lo que dice

y no demos vueltas a las palabras la realidad es esa este decía la señora consejera que ha sido sometido a información el proyecto constructivo que tiene importantísimas modificaciones no es conocido por los ciudadanos porque no se ha hecho publicación

está oculto para los ciudadanos y sin periodo de alegaciones

constructivo definitivo que tiene información y modificaciones importantes de tal manera que hay dos vías

quién ha podido hacer alegaciones a eso nadie no porque no se ha informado de eso por lo tanto

no hay información transparente de este proyecto nos hablaba la señora consejera del convenio de cuatro de mayo de dos mil seis convenio para el inicio de la implantación del tranvía en vitoria se refiere a un convenio de hace once años

se recoge este proyecto es de donde lo ha rescatado el gobierno oiga en once años cuántas

ninguna cero por qué después de once años sin haber impulsado los vecinos ni nadie del entorno la necesidad de ampliación del tranvía

y lo ponen en marcha por qué pues mire mi impresión es

eso es necesidad y dónde pues donde caiga

ningún beneficio para los ciudadanos que lo están explicando que no les atiende las necesidades de movilidad por lo tanto señorías es un proyecto rescatado por el gobierno con una urgencia no justificada atropellado una huída hacia delante sin ver las consecuencias no lo entendemos

y nos dice que es un acuerdo de dos mil seis algo hemos aprendido del dos mil seis aquí algo hemos aprendido y que en determinadas anchuras de calle

riesgo alto para los peatones y para los ciudadanos muy alto

donde los problemas casi todas las semanas hay un caso de alto riesgo casi todas las semanas entonces señorías de qué estamos hablando por qué nos empeñamos en esto porque no lo justifican la única justificación que dio la consejera es

no hemos aprendido nada pues la verdad que es una pena hemos aprendido algo

el tranvía sobre todo en algunas calles ahora resulta que cada vez que llueve la calle general álava además de tener el tranvía tiene un río que lo pueden ver ustedes

se ha modificado y se ha hecho una curva que se

es mucho más verde la vía del tranvía tenemos río y el tranvía pintado de verde eso es el green de esta infraestructura

esta infraestructura no no no queremos echar por tierra queremos evitar experiencias y situaciones muy negativas que se producen en determinados espacios del casco urbano esto no es green porque el tranvía sea verde

hay espacios donde pasa a ser un elemento agresivo

y es un peligro para los peatones por lo tanto señorías nosotros hemos presentado una moción que yo creo que es muy respetuosa con la infraestructura pero que pedimos que incorporen a esta tramitación sentido común y pedimos en la moción primero

de vitoria hasta que estén aprobadas las imprescindibles modificaciones del plan general de ordenación urbana y los tres planes sectoriales de vitoria gasteiz necesarios

termino de leer la moción y en segundo

no estamos en contra de la obra oiga vamos a estudiar se aplace el proyecto de ampliación del tranvía

y se estudie conjuntamente con el soterramiento de las vías de adif

y en el tercer punto pedimos que el proyecto de ampliación del tranvía

ferroviaria y aplique una distancia de al menos ocho metros con los edificios en las nuevas

creemos señorías señor lehendakari señores consejeros que esto tiene

y le pedimos el apoyo a esta moción muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

gracias presidenta y buenos días a todos efectivamente el asunto que hoy nos trae la señora lópez de ocariz en nombre del partido popular ya se ha debatido en el ayuntamiento de vitoria en varias ocasiones y en el parlamento vasco mediante una comparecencia y una interpelación

que se quiere concluir en no es un no al tranvía sino es un no a este proyecto de tranvía es lo que dijo la plataforma cuando compareció y es lo que hoy nos ha repetido la señora lópez de ocariz

por favor los carteles están prohibidos por favor los carteles están prohibidos

todos conocemos pero que desde luego el grupo socialista no comparte una es la no necesidad de este proyecto el despilfarro de la infraestructura el peligro de seguridad de los peatones

planteó mi grupo parlamentario uno el actual sistema de transporte público en vitoria

y otra es suficiente el sistema de movilidad existente hasta hoy en vitoria para poder responder a las necesidades ciudadanas

sorprende el no tajante con argumentos en nuestra opinión manipulados es cierto que existe un colectivo contrario al proyecto es cierto pero no se puede decir que los vecinos del barrio están en contra del proyecto porque no es cierto

pero también es cierto que hay dos asociaciones a favor de la llegada del tranvía al barrio de adurza es cierto que desde la administración se apuesta por una movilidad sostenible y es cierto que el tranvía es un medio de transporte público colectivo y sostenible

árboles afectados se reducirá el espacio de la calle y probablemente durante la puesta en marcha

pero también es cierto que para lograr el equilibrio entre el progreso y la defensa del medio ambiente que es lo que siempre hemos defendido aquí muchas veces existen afecciones

no atenta contra la seguridad ciudadana y que el beneficio de la puesta en marcha de este medio de transporte

más saludable y más sostenible además de esos apuntes entendemos

más importantes relacionados con este tema en el año dos mil ocho hay un acuerdo unánime en el foro de movilidad

en este plan aparecía de forma explícita la ampliación del tranvía a su paso por este barrio dos mil quince hay un acuerdo unánime en el ayuntamiento de vitoria unánime incluido el partido popular en la aprobación de un convenio de movilidad y en el año dos mil dieciséis hay una rectificación del acuerdo anterior y además de estas tres citas concretas señora lópez de ocariz

de una forma clara y sin intentar rebuscar dentro de lo complicado que puede ser la página web de una institución leo de forma textual año dos mil quince javier maroto anunciaba presentaré una iniciativa parlamentaria para exigir al gobierno vasco que exprese su voluntad de ampliar el tranvía de vitoria

que tanto usted como yo hemos nombrado aunque hemos explicado de forma diferente

y la verdad es que no sé si han cambiado mucho las cosas

de la ciudad era del pp y ahora es del pnv espero que no sea esta la causa de traer aquí un proyecto

porque ustedes no explican las cosas tal y como son se quiere supeditar todo al soterramiento cuando el partido popular igual que muchos otros partidos hemos hablado del soterramiento

y que ese informe al que tenemos que esperar para el dos mil diecinueve sea efectivamente favorable al proyecto vitoria necesita por un lado acercar la universidad a la ciudad

llega al campus de vitoria y ustedes lo saben perfectamente es el lugar a partir del cual se crearán las ramificaciones para poder llegar a los barrios de salburua y zabalgana esas necesidades que usted dice que no tenemos en cuenta

que apostamos todos por ella las dudas legales que se plantean como motivo para la negativa del proyecto fueron aclaradas respondidas y explicadas por la señora consejera

legal del proyecto el planteamiento que hace llegar el tranvía

responde a un planteamiento de proyecto de ciudad igual que para otras ocasiones se utiliza

y que desde luego no tiene como objeto principal conectar a estos vecinos con el centro sino con toda la ciudad no negamos posibles afecciones

un proyecto que acabe con el menor número de árboles posibles que entiende que la de aparcamientos será una realidad que responde

y por cierto durante el gobierno del señor maroto otras zonas de vitoria sufrieron que se le restará un montón de aparcamientos y ustedes lo defendían como algo

de la movilidad sostenible y sobre todo hablando de que el transporte privado

una iniciativa pública con oportunidad de financiación y de modernidad

que el gobierno vasco se hace cargo del sesenta y cinco por ciento la diputación del diecisiete coma cinco y el ayuntamiento el otro diecisiete coma cinco

cuando comenzamos las obras en el centro de vitoria también hubo reticencias por parte de algunos de hecho el tranvía hubiera llegado a vitoria mucho antes de cuando llegó si no hubiera sido porque hubo plataformas y mucha gente que se unió en el no al tranvía quizás si preguntamos hoy a la ciudadanía vitoriana

ampliamente positiva todos conocemos los datos de usuarios y todos o al menos casi todos seríamos capaces de enumerar

que hoy es una realidad consolidada y no cuestionada en la ciudad las preocupaciones iniciales de las líneas de autobuses la pérdida de aparcamientos los árboles con posibilidad de tala

han sido resueltas con el paso del tiempo porque también fueron planteadas en el primer proyecto del tranvía a su paso por general álava es verdad que todos los sistemas de transporte algún problema problema que se intenta evitar o minimizar desde la perspectiva de un planteamiento global de interés general de diseño de ciudad por eso la explicación la defensa o crítica no debiera ampararse en lo que me afecta a mí la distancia de mi parada dónde me deja de cerca del hospital

también hubo quejas por parte de los ciudadanos del centro de vitoria que se quejaban

y el tranvía les hacía andar unos metros eso también ocurrió y hoy desde luego están encantados con poder utilizar el tranvía a diferencia de otros barrios

de transporte público en la ampliación de un proyecto de movilidad sostenible en la interconexión de ciudadanos

terminaré esta primera intervención con algunas conclusiones los socialistas vascos apostamos por un transporte sostenible dentro de un marco ya definido de movilidad sostenible

en esa visión que le digo visión de ciudad nos mantenemos en los acuerdos unánimes tomados en el ayuntamiento por parte de todos los grupos políticos que forman parte de la corporación municipal entendemos que cualquier proyecto que lleve a cabo una administración velará por ser el más apropiado más respetuoso y más eficiente creemos que no deben utilizarse juicios para la defensa o la crítica de un proyecto porque no son todos los ciudadanos de adurza los que están en contra del proyecto hay un colectivo que sí y dos colectivos que están a favor y reconozcamos que hay muchos ciudadanos que no forman parte de colectivos el tramo del tranvía del que hablamos hoy

pretende ser una ampliación del tramo actual a partir del cual continuar con su crecimiento hacia los barrios de salburua y zabalgana que son dos de los barrios nuevos puesto que el otro barrio nuevo lakua ya está conectado el tranvía en vitoria es un medio de transporte defendido apoyado utilizado y consolidado

por la sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente la misma preocupación que tenía el señor maroto cuando era alcalde de vitoria y que parece que hoy solo se preocupaba el partido popular

utilizando líneas argumentales no reales que lejos de solucionar problemas crean falsas expectativas y frustraciones en la ciudadanía en este caso la ciudadanía vitoriana del barrio de adurza y termino señora presidenta

por qué nos empeñamos en continuar con este proyecto pues nos empeñamos porque creemos que es necesario para la ciudad porque tenemos un proyecto de ciudad porque no cambiamos de opinión en función del alcalde si es de nuestro ramo o no porque atiende a la movilidad sostenible porque es la ampliación para poder cubrir las necesidades de salburu y zabalgana y por todo ello votaremos

utilizando a los colectivos para intentar acabar con un gobierno municipal que como sigan así creo que será difícil que lo recuperen eskerrik asko

que este tema de la ampliación del tranvía a vitoria gasteiz haya tenido que llegar hasta este parlamento pero es evidente que cuando las cosas se hacen mal siempre tienen posibilidad de acabar peor como parece ser este el caso es evidente que toda infraestructura

que siempre va a generar algún tipo de oposición en aquellos vecinos y vecinas que se sientan perjudicados por el trazado o que sientan que

pero lo que ya no es tan habitual es tener un grado de contestación vecinal como el que está suscitando este proyecto que lleva ya más de cuatro mil firmas en contra y estas firmas evidencian que

a nadie se le escapa tampoco que este rechazo civil posiblemente habría sido menor si la ciudadanía hubiese percibido la existencia de un consenso político en torno a la materia pero es evidente que algunos grupos decidieron acabar con este consenso hace un año y romper los acuerdos que existían en torno al desarrollo de las infraestructuras de movilidad en la capital

el resultado conflicto y controversia donde debería imperar el consenso y el acuerdo porque la decisión de dar prioridad a la ampliación del tranvía hacia el sur en lugar de hacerlo en la dirección

y que además se tomó con prisas sobre la base de un proyecto de ampliación elaborado sobre las bases del plan de movilidad de dos mil ocho cuando realmente podría haber esperado al informe

de igual manera prisas en cuanto a que el proyecto de ampliación podría haber esperado igualmente a conocer el resultado de los acuerdos definitivos que se vayan a dar en materia de soterramiento del ferrocarril porque sin duda van a transformar en gran medida la movilidad del sur de la ciudad y además por la magnitud que van a tener una y otra obra es evidente que deberá ser

y esas prisas en la fase de planificación también se han trasladado a la fase de ejecución

rechazando la mayor parte de alegaciones y propuestas que ha realizado el vecindario cuando

de esta infraestructura en aquellos puntos más conflictivos pero no voy a terminar mi intervención sin

está fuera de ordenación algo insólito sin duda y aún más insólito el hecho de que haya voces que defiendan que este proyecto pueda seguir adelante sin esperar a la tramitación de la modificación del plan general de ordenación urbana evidentemente estas

pero de alguna manera esa irresponsabilidad aboca al proyecto a una situación de inseguridad jurídica cuanto menos preocupante

el proceso de modificación del plan general de ordenación urbana va a terminar recurrido en los tribunales

sobre el proyecto es cuanto menos improcedente y llegado a este punto quiero pedir al grupo proponente que nos permita votar su moción por puntos porque coincidimos con algunas de las peticiones que

pero no querría terminar sin decir claramente que desde elkarrekin podemos sí defendemos el tranvía de vitoria gasteiz sí defendemos su ampliación pero en el sentido este oeste

el que implique un menor impacto social y ambiental y que evidentemente ese impacto social y ambiental se debe consensuar con la población de los barrios afectados porque hoy en día ese impacto mayor o menor está provocando el enfado y la oposición ciudadana y la respuesta de las instituciones no puede ser la de mirar hacia otro lado y obviamente en todo este asunto lo que sí rechazamos

con las que se está cometiendo el proyecto hasta abocarlo como he dicho a una situación indeseable de inseguridad jurídica a futuro muchas gracias

yo no sé yo si tuviera que hacer lo que está haciendo usted la verdad es que me pondría bien colorado porque estar hablando hoy de conejos de la chistera de proyectos no demandados de un proyecto peligroso como ha dicho usted como si

después de lo que se ha navegado y después de lo que ha navegado el partido popular en este tema pues la verdad es que el resultado poco menos que sorprendente yo por lo menos estoy sorprendido y me imagino también

y consejera hace un año estará también sorprendida porque el bandazo que ha dado usted en muy poco tiempo pues es cuando menos sorprendente usted

el pleno de control del ocho de abril del dos mil dieciséis

de la ampliación sur del tranvía usted inauguró

nunca es tarde si la dicha es buena o más vale tarde que nunca más vale tarde que nunca que sí se hiciera el proyecto

en el ayuntamiento de vitoria porque el pnv eligió mal entiendo que se refería a nosotros un mal gobierno para la ciudad un gobierno para la ciudad de vitoria

y sabe dónde está la piedra en esa camino refiriéndose a nosotros

entonces señora consejera no habrá vías de propaganda electoral cuando sabe que no son viables ojalá lo sean ojalá se hiciera el tranvía y en el dos mil dieciséis estábamos hablando del mismo trazado que pasaba por el puente de las trianas y que llegaba

porque eso ya lo anunció javier maroto en febrero del dos mil quince puente de las trianas en dos mil dieciséis puente de las trianas y ahora resulta que este es

y es horroroso y esto no vale para nada yo insisto me pondría rojo de vergüenza si tuviera que decir lo que ha dicho

se hablaba de los nuevos retos a los que se enfrenta vitoria gasteiz cómo está relacionado con la gestión de la movilidad y tal y hablaba de las tendencias que hacían una ciudad más sostenible o menos sostenible digo en cuestiones de movilidad entonces había unas causas de fondo que decían

que hay una tendencia a seguir utilizando el automóvil por ejemplo y estaba claro estaba claro que hay otros elementos que son superiores no solo ya al barrio de adurza san cristóbal gasteiz sino una cuestión global que hay que añadir unos problemas se dice en el diagnóstico

las políticas urgentes de reducción de los gases de efecto invernadero reducción de contaminación atmosférica ruido etcétera etcétera y decían que el futuro

con un cambio de reparto en la modalidad haciendo hincapié en andar la bicicleta la movilidad colectiva pública a poder ser eléctrica

de nuestra posición que yo creo que están suficientemente fundamentadas

un análisis de alternativas de comunicación en el eje este centro oeste

el estudio para la extensión de las actuales vías del tranvía y

o ampliación de tranvía no se trata de una manera de hacer política fuera de toda razonabilidad

aprovechadora del momento coyuntural no es ni siquiera populismo es desecho político voy a contarles una historia o si quieren un cuento pues no estamos hablando de una idea que se le haya ocurrido en una noche de insomnio a un técnico desequilibrado no estamos hablando de una idea de ampliación de tranvía

y vendió a un señor que era alcalde y que se llamaba javier maroto y que se le ocurrió el día nueve de febrero de dos mil quince señalando que se trataba de

una inversión razonable en plena crisis pocos meses después hubo elecciones

quién salió elegido alcalde en aquella primera reunión de concejales electos una vez pasado el verano y sosegados algunos ánimos el que había pasado a ser

maroto en el debate del uno de octubre del dos mil quince en el que el nuevo alcalde urtaran presentó sus proyectos de legislatura

señaló que se sumaba al proyecto de ampliación del tranvía de angulema a la universidad cómo no si la idea era suya y terminó exigiendo

y que el ayuntamiento la diputación y el gobierno presupuestaran lo necesario porque si no y cito otra vez textual su apuesta no será creíble

y dicho y hecho en los presupuestos dos mil diecisiete aparece una partida

con las subsiguientes partidas de crédito compromiso hasta el año dos mil veintiocho cuyo título genérico en la partida presupuestaria es ampliación tranvía gasteiz y por mucho que he rebuscado no he encontrado que absolutamente ningún grupo parlamentario de esta cámara

o sea hace solo setenta y nueve días fueron aprobados tales presupuestos

y por tanto implícitamente aceptada por la unanimidad de esta cámara con el voto a favor de los socios del gobierno y la abstención del partido popular de ustedes

eta baztertzeko digamos que pasaron en veinticuatro horas de un tranvía llamado deseo a no sé a aquellos chalados en sus locos cacharros o a parque jurásico de golpe

un giro de tal dimensión debería causarles por lo menos alguna lesión en las meninges

en la de la ideología y en las neuronas de la estrategia pero no no les ocurre nada porque esa zona del pensamiento pues se ve que no la usan

del posicionamiento a corto que es la zona de no pensar de actuar en función de y en este caso de aprovechar la coyuntura del momento y mañana

qué otra posición cogemos puedo entender en parte que la entiendo el posicionamiento de algunos vecinos

dudas e inseguridades que pueden llevar a posicionarse que siempre posicionarse por si acaso a la contra lo que no se entiende lo que no se entiende para nada es que un partido que impulsó animó exaltó

para revelarse totalmente en contra lo más original de su neoconversión es que lejos de criticar exclusivamente la ampliación prevista hoy ya lo ha hecho y el otro día en la comparecencia se dedicó a poner verde

gran parte del tranvía ya finalizado y puesto en marcha hace años y que fue aprobado y alabado e inaugurado por su grupo municipal se ha olvidado que alfonso alonso y javier maroto han sido alcaldes de gasteiz

lo defendieron y planificaron su ampliación que incluía como ya le he dicho antes el actual trazado a la universidad dicho lo dicho pues parece que no haría falta más

si recuerdo sus alegaciones de carácter técnico jurídico que es la que utiliza para intentar justificar independientemente de que se trate de esa disculpa pues no voy a reiterar las profundidades técnicas en las que ya se adentró en la comparecencia o en la interpelación

porque la consejera de desarrollo económico ya se lo explicó y usted lo sabe tanto ante la legislación sectorial ferroviaria como ante todos los instrumentos de ordenación del territorio el proyecto se encuentra en orden solo como una muestra le citaré el escrito que remite el arquitecto jefe

del servicio de espacio público y medio natural del ayuntamiento de vitoria al director de infraestructuras del transporte el nueve de marzo

reza así el proyecto presentado se adecúa en sus aspectos generales y principales al estudio informativo de ampliación del sur del tranvía de vitoria gasteiz primera fase por lo que desde el punto de vista técnico puede aprobarse el proyecto

no obstante a lo anterior consideramos que podría ser conveniente valorar y considerar una serie de aspectos menores que luego listo y que por su entidad no impiden

pues hombre usted también sabe que el ayuntamiento se ha comprometido en ello sin que resulte

pues previamente ya se habían aprobado los correspondientes estudios informativos como tampoco resulta necesariamente imprescindible desmontar todo el tranvía ya construido e inaugurado porque

ahora que el ayuntamiento de ahora va a tener que poner orden en lo de ahora y en lo de antes porque los anteriores alcaldes

pues hombre no se fijaron en lo que les tocada hacer y es que todo en esta batería de iniciativas

interpelación y la presente moción no dejan de ser la escenificación en definitiva de una postura populista y electoralista usted sabe que la va a perder lo sabía desde el principio que la iba a perder ni siquiera se ha dirigido a nosotros para ver

porque además escuchó las posiciones en la comparecencia

ante posibles clientes su postura discrepante

radical de la que ha venido manteniendo de toda la vida del señor ante el tema del tranvía

lo peor es que vuelven a la carga con el método de romper cualquier consenso social en gasteiz con cualquier

no hay manera de lograr una cohesión ante proyectos de ciudad que logren una identificación social

que saque lo mejor que tenemos la sociedad gasteiztarra para avanzar

que se revela cada día más imprescindible se empeñan ustedes una y otra vez en romper la cohesión en buscar grietas en los acuerdos en tensionar la sociedad les da igual la rgi que un tramo de mil cuatrocientos metros de un tranvía les da igual

para intentar sacar rentabilidad electoral envenenar para rentabilizar es la única explicación y lo mismo que es legitimo cambiar de opinión

opinativos coyunturales como colofón y para que no se relaje porque le voy a citar frases

la primera es de alguien que hace tiempo que no se traía a esta cámara porque desaparecido

que dijo el populismo es la democracia de los ignorantes y otro

dijo el populismo es el camino de la autodestrucción de la democracia y esto es mío

una variante del populismo es abandonar una idea estructurada

cuántos concejales tiene el grupo popular en el ayuntamiento de vitoria

señor tellería sabe usted perfectamente que no estamos hablando del mismo proyecto que el proyecto del dos mil quince y el de hoy no tiene nada que ver

ahora son dos que el proyecto del dos mil quince no modificaba el puente de las trianas y este lo aumenta en catorce

que entonces no estaba el soterramiento y hoy sí señor tellería pero de qué quieren hablar

por lo tanto señor tellería me hablaba de informes del ayuntamiento de vitoria mire decía

pública del ayuntamiento de vitoria decía durante los años de explotación de las actuales líneas de tranvía

denuncias vecinales por molestias ocasionadas por su funcionamiento en diversas zonas del recorrido especialmente angulema general álava y algunas calles de abetxuko

zonas donde más estrechas son por lo tanto esto es así y decía las quejas principales son por ruidos especialmente vibraciones en viviendas y locales comerciales hay también ciudadanos que reportan mal funcionamiento de equipos informáticos y de diagnóstico médico que achacan a las vibraciones línea eléctrica o subestaciones energéticas de la atención de todas estas denuncias y de las comprobaciones realizadas se deriva la necesidad de la que la ampliación de la línea del tranvía se realice

de las medidas correctoras y se estudie esta casuística señor tellería no nos inventamos nada esto es lo que escriben los técnicos

y yo lo que le voy a decir es que no cometamos los errores que hemos cometido

a tiempo de no volver a equivocarnos porque volver a cometer los mismos errores supone

para los vecinos y este proyecto no tiene nada que ver se lo digo al grupo de eh bildu

tanto es así que dobla la vía donde había una hay dos por lo tanto este proyecto constructivo

no lo conocen los vecinos les parece bien

que les parece bien que se cometan todos estos atropellos les parece bien respeto su opinión

los hechos son los que son les parece bien a cambio de qué

les da igual mire decía el señor zorrilla ayer en una comisión

martes el martes decía las prisas son malas consejeras

las prisas son malas consejeras hay que tener en cuenta la opinión de los vecinos hay que evaluar la demanda eso también lo decía bildu necesidad de analizar y evaluar la rentabilidad analizar la demanda

cuarenta y ocho horas no llega pero quién hace travestismo aquí

señorías la verdad es que es muy triste tener que asumir la responsabilidad

caiga quien caiga les da igual como si llevasen orejeras y un antifaz una huída hacia adelante sin mirar las consecuencias porque aquí faltan estudios e informes de demanda porque este tranvía no solo no acorta los tiempos

está en el centro de vitoria este tranvía no solo acorta los tiempos de desplazamiento a la universidad sino que los alarga

que utilizando el recorrido del tranvía porque han hecho un recorrido

señorías es que no hay otra justificación que no tiene otra justificación señorías

el otro día la señora consejera nos hablaba del metro en un metro cabe la actividad de un barrio pero señorías cómo se puede decir una cosa como esa porque cuando una línea de tranvía pasa una cosa como esta por ejemplo

cómo se atiende esto en un metro qué consecuencias tiene esto en un metro cómo se resuelve señorías creo que esto requiere

y que se tenga en cuenta cuál es la realidad de la infraestructura y la realidad de la estructura donde lo van a meter o encajonar este tranvía creo que es necesario que tengan en cuenta
las demandas de los vecinos y de mucha más gente de vitoria amaitu mesedez gracias señora consejera eskerrik asko

gracias presidenta mire no por repetir algo acaba siendo verdad y como en vitoria hay algo que se habla mucho en la ciudad que es eso de ser vtv que somos los de vitoria de toda la vida les voy a poner unos ejemplos para que ustedes vean señor becerra y señora lópez de ocariz

para que vea que tenemos en cuenta el grado de respuesta vecinal porque yo sí pongo en valor el trabajo que hacen los colectivos que se implican en la política de las ciudades

no sé si recordarán el proyecto de las escaleras mecánicas en el casco medieval de vitoria la planta de recogida neumática en el barrio de coronación el proyecto de modificación de la virgen blanca el propio tranvía que llegó diez años tarde que primero nos hubiera salido gratis y que luego tuvimos los vitorianos que pagar la reforma de la calle sancho el sabio

besarkada etxea la bronca que hubo en la ciudad para la implantación de la misma

pero tenemos que reconocer que es una ciudad que cuando se pone un proyecto sobre la mesa

nos cuesta y lo digo yo que vivo en ella y que me considero vtv de esas que dicen en la calle

y la planta de recogida neumática que puso en marcha el señor pizarro del partido popular en el ayuntamiento de vitoria y la casa del sida que la puso en marcha el señor cuerda cuando era alcalde de vitoria digo que hay ejemplos

se escucha a la ciudad se tiene en cuenta la opinión de los vecinos pero cuando alguien tiene responsabilidades políticas tiene que gestionar y entender que tiene que proponer herramientas que mejoren la vida y la calidad de vida de los ciudadanos

y esto es lo que ocurre en vitoria y seguro que ocurre en otras ciudades pero no digamos que las cosas se deben de paralizar porque haya un colectivo que quiere paralizarlas hay que escuchar

no se puede mentir y no se puede faltar a la verdad y sobre todo no se puede cambiar de criterio cuando no tiene el alcalde y cuando deja de tenerlo que es lo que hace el partido popular

y usted erre que erre con que la universidad ya está en el centro pero si nadie discute

ni es barcelona ni siquiera es valencia tiene el tamaño que tiene y todos sabemos que la universidad lo único que le aleja del centro es las vías del tren esa que el partido popular nos ha dicho que nos la va a soterrar y fenomenal le alegraremos y yo le aplaudiré a usted cuando veamos el soterramiento que dice el partido popular que va a hacer

para llevar la universidad al centro que no que es porque se alarga el tramo del tranvía para a partir de ahí crear los ramales que lleguen a las otras dos partes de la ciudad

hacerlo para hacer obra pública porque puede usted ir a las hemerotecas del propio ayuntamiento de vitoria por qué calles el partido popular proponía que el tranvía que hoy tenemos en angulema tenía que ir hablaban de la calle florida sí o no hablaban de los herrán sí o no de la calle josé mardones sí o no era más largo o más corto traiga el metro que nos trajo el otro día y miramos cuál era la distancia hombre

mire señora lópez de ocariz no tiene razón y usted para eso intenta se lo ha dicho al señor

efectivamente el partido popular tiene muchos concejales en el ayuntamiento de vitoria más que el pnv

pero la política no es únicamente ganar elecciones señora lópez de ocariz es ser capaz de pactar de llegar a acuerdos y de sumar ustedes pueden seguir teniendo más concejales que si se quedan solos

es que esa es la política la capacidad de llegar a acuerdos de la que el partido popular en vitoria

porque juegan con cosas que son muy importantes para la ciudadanía

y que también se preocupa de que se llegue a debates manipulando los sentimientos de la ciudad como usted sabe que fue

y usted decía que le parecía triste todo esto a mí lo que me parece triste es que se utilice

de algunos colectivos de la ciudad cuando usted sabe por qué se hace el tranvía es igual que yo de vitoria y sabe que necesitamos ampliarlo

a un punto concreto de la ciudad para poder crecer a los otros barrios y lo sabe usted igual que yo y también sabrá que hay estudiantes universitarios que cogen el tranvía en puntos de la ciudad pero que muchos llegan a la nueva estación de autobuses

y termino diciendo el tranvía es necesario colectivo público y sostenible tan público colectivo y sostenible que defendía el señor maroto

que hay que escuchar a los ciudadanos pero no hay que esconderse detrás de los ciudadanos para hacer política porque a nosotros nos eligen para gestionar

pero la responsabilidad de las decisiones es nuestra y por eso les digo

con alcaldes de todos los partidos políticos había que haber parado todo eso

no creemos falsas esperanzas a los ciudadanos y hagamos política con ideología y no con los populismos que parece que están muy de moda eskerrik asko

bai bertatik becerra jauna sí solamente es para pedir la votación por puntos de los dos primeros

no solamente decir que yo creo que visto los términos del debate y visto las

que trae el partido popular no merece la pena

en el despropósito de argumentación que yo entiendo que usted ha hecho y en este gran bandazo

después de haber presionado porque no se estaba llevando a cabo después de haberlo apoyado vía presupuestos ahora de repente estar

de una parte de los vecinos de adurza y san cristóbal para retorcer el relato de lo que ha pasado con el tranvía no merece la pena insistir

actuación y que entendemos que los tres proyectos más importantes de movilidad

que están encima de la mesa ahora en juego que son la ampliación del tranvía

y el eje este oeste que para nosotros en principio arabatran es la mejor opción a la espera de que se demuestre en el estudio de alternativas

entendemos que es el todo lo que hace comprensible esta parte entonces mantenemos por ahí la postura pero desde luego
a un debate deshonesto no queremos entrar eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak

efectivamente el partido popular tiene más concejales que el pnv en el ayuntamiento de gasteiz le voy a hacer una pregunta retórica porque no va a tener tiempo de contestarla porque ya no tiene oportunidad sabe

pues eso el otro día tuvimos una comparecencia

en que vino un grupo de profesores de la universidad

una argumentación teóricamente científica y técnica

y yo les dije que la premisa de partida que utilizaban

en una reunión en mil novecientos noventa y cuatro en bruselas de los grandes constructores de esa reunión se sacó la conclusión en la unión europea

que teóricamente desvirtuaba todas las conclusiones que pudieran surgir en ese estudio usted hoy ha dicho que la única razón porque se quiera hacer el tranvía es porque se quiere hacer obra pública

en una voz del partido popular pero bueno ese apriorismo vuelve a ser exactamente igual es decir ese

también ha dicho una cosa que no permite el paso de bomberos y ambulancias mentira y no venga a mentir eso para empezar matice las cosas diga

es mentira y estamos otra vez ante lo mismo que le he dicho antes ante una postura permanente del señor maroto y del partido popular en el ayuntamiento defendiendo este tranvía mire yo no sé si era exactamente el mismo con un

pero el proyecto que ustedes aprobaron en el presupuesto en abril de este año

ya era ese proyecto ustedes lo aprobaron en los presupuestos de esa no se puede escapar ese era el proyecto que se va a construir hace dos meses y dice además que está envejeciendo mal

sabe cuántos usuarios ha tenido el tranvía en siete años

cuarenta y ocho millónes cuarenta y ocho millónes de usuarios en siete años siete millónes de usuarios por año eso es lo que quiere la ciudadanía de vitoria su tranvía siete millónes de usos

es desde el dos mil quince que lo aprobó su alcalde sugirió el proyecto en febrero del dos mil quince en otras cosas hubiese dicho que lento porque además claro dice esperen al soterramiento yo le voy a preguntar está usted convencida de que va a haber soterramiento

es como los ojos del guadiana lo tuvimos nos lo quitaron

y con eso por lo menos para la lluvia quedábamos tapados ahora

hasta que no lo vea no lo creeré y por tanto en ese momento se podrán tomar otro tipo de decisiones y no podemos esperar a la movilidad sostenible de esta ciudad a ver si el que manda en el gobierno de madrid

de no sé qué grupos parlamentarios eso o está hecho o no podemos planificar la movilidad sobre algo que no sabemos si se va a hacer

y sin más volver a recordarles que se miren

cambios ideológicos y de opinión sobre la movilidad porque de verdad un esguince neuronal van a tener en cualquier momento muchas gracias

josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

el pasado día dieciséis interpelamos a la consejera de desarrollo económico acerca del convenio subscrito

para la construcción de la variante sur ferroviaria por parte del gobierno vasco

en esa interpelación solicitamos a la consejera que nos aclarase algunas de las incógnitas de las muchas incógnitas que persisten en torno a este proyecto y que preocupan a la ciudadanía de los municipios del gran bilbao que pueden resultar afectados por la construcción de esta infraestructura

consideramos que la variante sur ferroviaria es una infraestructura interesante por dos motivos en primer lugar porque evita el tránsito

con la consiguiente reducción de molestias ruido y de los riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas y en segundo lugar porque permite trasvasar las mercancías

que es una tendencia que debe convertirse en uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático en el ámbito del transporte sin embargo el proyecto presentado en dos mil quince por el ministerio de fomento comportaba una serie de impactos ambientales y sociales considerables a lo largo de su trazado

a la vista de estos impactos y de la alarmante falta de información que rodea ahora mismo a este proyecto para nuestro grupo

alinearnos con los colectivos afectados y tratar de sacar rédito electoral de la torpeza con la que las instituciones habitualmente suelen gestionar este tipo de infraestructuras sin embargo optamos por la vía más costosa desde el punto de vista político

y en última instancia la de consensuar un texto común y compartido que hoy presentamos ante este pleno y en el que se recogen nuestras ideas y propuestas en dos sentidos

al impacto social y ambiental que conlleva la puesta en marcha de la variante sur y en segundo lugar para conseguir que esta infraestructura sea complementaria con las otras redes de ferrocarril construidas o ya proyectadas este ejercicio de acercar la política a los problemas de la calle y tratar de aportar soluciones

como extraordinario y sin embargo lo es hablar con la gente y consultar

pretende acometer una gran infraestructura y sin embargo las instituciones huyen de hablar con la gente que expone los problemas como si la propia gente fuese un problema

el proyecto presentado por el gobierno central en dos mil quince suscitó un gran número de quejas y alegaciones que aún no han sido respondidas por el ministerio por lo tanto no parece lógico

a las demandas planteadas en su día por la sociedad civil y por las instituciones y tampoco parece razonable que el gobierno vasco suscriba el convenio que ya ha acordado

para minimizar el mencionado impacto social y ambiental pues bien cuando hemos intentado llegar a una transacción con los grupos que apoyan al gobierno se nos ha trasladado que esa transacción no es posible porque el apoyo al convenio de encomienda que solamente está acordado no está firmado irrenunciable es decir que en pocas palabras nos queda bien claro que el proyecto de la variante sur ferroviaria ya está atado y bien atado en los despachos y que cualquier ejercicio de acercamiento a la ciudadanía como el que hemos hecho para conocer sus problemas o cualquier aportación constructiva que se quiera hacer desde los grupos políticos de la oposición

esa política de moqueta y esa forma de promoción política que consiste en vender acuerdos a golpe de fotografía y titular aunque detrás no haya nada también tiene sus víctimas y en este caso las víctimas son la gente de la calle la que no tiene arte ni parte ni en el acuerdo ni en la fotografía pero que en el caso de las grandes infraestructuras

y esto es lo que va a pasar con la variante sur ni más ni menos es muy fácil pintar una raya sobre un mapa y decir la variante pasará por aquí pero en el caso del barrio de gorostiza de barakaldo

que se eleva apenas a siete metros del suelo y por el que circularán todos los días

y en el caso de los barrios bilbaínos de la peña y abusu o el municipio de basauri

van a suponer que durante un número indeterminado de años pero muchos

de diecinueve a setenta y dos convoyes diarios cargados con

incluidas las peligrosas para el caso de los municipios de bilbao y basauri nuestro grupo

de que el tráfico de mercancías pueda discurrir a través del túnel de acceso de la y vasca al municipio de bilbao de esta manera no solamente se evitaría el tránsito de los convoyes por estos términos municipales de bilbao y basauri sino que se buscaría hacer complementaria

ferroviarias para evitar duplicidades y el gasto

pues bien también en este caso ha sido imposible la transacción

que la imposibilidad viene orientada por el veto que se le ha impuesto al departamento de desarrollo económico y que tenga más que ver

comenzásemos a planificar de forma racional nuestras obras públicas

y años más tarde horadar otro en paralelo a pocos kilómetros para la fase dos de la variante sur

que se podría evitar si hubiera voluntad política que visto lo visto no la hay erdibidekoa izan ala ez bariantearen kasuan

en resumen con transacción o sin ella desde elkarrekin seguiremos defendiendo el derecho de la ciudadanía afectada a tener una respuesta satisfactoria de las administraciones a sus demandas de información a sus quejas y a sus alegaciones presentadas en su día tanto por particulares asociaciones y entidades de la sociedad civil como por las administraciones locales por cuyos términos municipales va a discurrir la variante

y para fomentar la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para reducir el impacto social y ambiental y con transacción o sin ella desde elkarrekin seguiremos propugnando que se acabe con los gastos innecesarios y las duplicidades en la construcción de infraestructuras y que la variante sur sea complementaria con la red ferroviaria de adif y con la y vasca para que pueda justificarse su viabilidad económica

señor becerra yo en su moción

ustedes dicen que el objetivo de la variante sur ferroviaria es agilizar la salida de mercancías del puerto de bilbao evitando los núcleos urbanos lo cual es correcto dicen

dicen hombre no parece lógico que el gobierno vasco retome obras no retoma nada hay que ir por los pasos que hay que ir que es lo que está previsto dice usted

que el planteamiento de la variante sur agrava el paso por bilbao y basauri con lo cual yo ya no sé si está a favor o está en contra de la variante sur pero

que se debe estudiar la posibilidad de habilitar y conectar el túnel de basauri bilbao

parece correcto que se estudie yo no sé si eso es viable si es compatible o no es compatible pero me parece lógico que se estudie pero luego usted qué nos plantea

es primero le parece bien que salgan del núcleo urbano los trenes de mercancías pero luego nos dice quietos parados todos hasta que no haya un estudio de viabilidad oiga la prioridad es sacar las mercancías de los núcleos urbanos o no

que no se hace porque es que llevamos esta semana hablando de trenes diferentes trenes diferentes sitios cuando no hablamos del tranvía hablamos de los trenes en bilbao o en erandio y depende quién presente las cosas dice que bueno el tema económico hay que mirarlo de aquella manera

entonces aquí yo encuentro una contradicción ustedes nos piden que el gobierno vasco

y hay demandas y alegaciones contradictorias entre sí habrá que estimar unas y desestimar otras

que se haga con el mayor consenso posible de todo el mundo como se recoge en la enmienda transaccional

a lo siguiente porque usted nos dice primero que habría que estudiar esa posibilidad

que el parlamento vasco considera que es imprescindible que la variante sur esté conectada desde el principio

y ahora ya tiene que ser porque sí sin estudiarlo

y a partir de aquí el punto cuatro el cinco y el seis de su propuesta

nosotros yo tengo mis serias dudas de que estén a favor del proyecto no sé si están a favor del proyecto o no están a favor del proyecto yo le digo que su exposición de motivos

vamos o menos correcta que hay que estudiar más posibilidades sí y se está en esa fase

a usted no le gusta la encomienda de gestión que se ha acordado pues bueno bien

cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus preferencias la encomienda de gestión de las obras previamente se tienen que acabar todos los estudiar y a lo mejor sí hay que variar parte de ese trazado que está hoy previsto no sé por qué usted se empeña en que va a ser así y le voy a recordar una cosa

y hace treinta del túnel del serantes que era la panacea de la solución a la salida de mercancías del puerto de bilbao

no había habido disponibilidad o interés real en hacerlo

y así sigue el túnel del serantes para salir las mercancías del puerto de bilbao

están tapiados entre un sitio y otro más de sesenta millónes de euros

de que en fin se dé salida a esas mercancías del puerto de bilbao que mejore la competitividad del puerto de bilbao y procurar sacarlo de todos los núcleos urbanos posibles en eso supongo

con las cosas que nos ha dicho aquí yo parto de la base de que todos planteamos lo mismo y todos queremos lo mismo y todos queremos que se haga con el mayor consenso posible ahora tengo mis dudas de que ustedes estén en eso por el discurso que nos ha hecho

nada tiene que ver ni con su exposición de motivos ni con lo que usted planteaba nos habla de los despachos las obras los constructores

pero lo que sí estamos es en favorecer la salida de las mercancías por tren porque además es lo más ecológico y sostenible del puerto de bilbao va a ser

y desde luego si se consigue liberar en santurce principalmente

a la ría y al mar de todos los núcleos urbanos el transporte de mercancías sean peligrosas o no pues a nosotros nos parece que ya va siendo hora que después de treinta años que llevamos con este tema se empiece hacer algo que mejore la calidad de vida

de todos los residentes en la margen izquierda y parte de bilbao eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak andueza jauna

eskerrik asko mahaiburu anderea en fin yo no voy a

que ha puesto encima de la mesa el señor damborenea con las que estoy perfectamente de acuerdo la primera pregunta

están o no están de acuerdo con este proyecto yo le puedo decir que mi grupo parlamentario

y no lo está actualmente lo ha estado siempre desde un inicio porque nosotros también hemos participado en el impulso de este proyecto por qué pues porque consideramos que es un proyecto estratégico y fundamental

entendemos que de alguna manera le da soporte a parte o a gran

país y permite de alguna manera ser más competitivos por tanto entendemos que es una infraestructura más que necesaria

viabilidad incluso del puerto de bilbao por tanto nosotros siempre lo hemos apoyado a pesar de que el señor damborenea ha dicho ciertas cosas de nuestros gobiernos creo que esos gobiernos siempre han estado firmemente comprometidos con esa parte del proyecto que ustedes han mencionado sino con el proyecto en su totalidad como lo ha estado siempre con otro tipo de infraestructuras a las que también mencionaba el grupo elkarrekin podemos en su

inicial por tanto nosotros mostramos nuestra satisfacción por el convenio que se ha firmado nosotros lo respaldamos como no podía ser de otra manera porque este desbloqueo supone impulsar un proyecto como decía nosotros consideramos

y fundamental como un proyecto de país por tanto entiendo

fruto del diálogo fruto de la negociación fruto del consenso también aporta cuestiones muy positivas en argumentos que ponía encima de la mesa el señor

se compromete a redactar un proyecto de impacto ambiental y porque por otro lado va atender o va a responder a las reivindicaciones a las alegaciones

se han venido realizando instituciones y colectivos en los que también han estado

alcaldes socialistas que han realizado alegaciones que han puesto encima de la mesa problemáticas por tanto estamos satisfechos de que ahora en este punto esas alegaciones cuando menos sean estudiadas sean respondidas de la manera más satisfactoria posible y atendiendo al interés general no al interés particular de uno

siempre lo hemos hecho desde el compromiso ni lo hemos hecho desde la pancarta ni sacando pecho por algo que venimos haciendo de manera cotidiana que es hablar con nuestros ciudadanos

canalizar esas demandas canalizar esas preocupaciones a través de nuestros ayuntamientos nosotros siempre nos hemos reunido con esos colectivos no ahora desde un inicio desde hace treinta años como decía hemos canalizado

las hemos hecho nuestras porque algunas incluso eran de autoría de nuestros propios alcaldes por tanto me parece muy bien que ahora venga usted

el defensor de esas reivindicaciones pues bien pues bienvenido otros llevamos haciendo casi cuarenta años pero en fin sí me gustaría que se pronunciara sí me gustaría que se pronunciara están ustedes a favor

les parece adecuada no les parece adecuada aporten soluciones sí pero no de trazo grueso porque algunas de las soluciones que ustedes han puesto encima de la mesa

y con algunas estarán de acuerdo algunos ayuntamientos y con otras no por tanto la visión tiene que ser mucho más global

si me lo permite y tiene que venir no de la mano de algunas reivindicaciones sino a través del diálogo entre instituciones

que están poniendo los problemas encima de la mesa por tanto no pongan el carro por delante de los bueyes siéntense sean proactivos en la colaboración inter institucional en la colaboración política

con el ánimo constructivo de encontrar soluciones globales ahora bien a mí qué quieren que les diga hay cosas que me parecen bastante contradictorias muchas de ellas las ha puesto encima de la mesa en señor damborenea por tanto no voy a incidir pero ha habido una que concretamente me ha llamado mucho la atención

ponen como solución como piedra angular de esa solución el poder utilizar el tren de alta velocidad y yo creo que su grupo siempre ha estado en contra del tren de alta velocidad por tanto el tren de alta velocidad es poco menos que un atentado contra este

ponen como gran parte de la solución la utilización de ese tren de alta velocidad por tanto dos preguntas están ustedes de acuerdo con la variante sur ferroviaria y segunda están ustedes de acuerdo con el tren de alta velocidad y su utilización es evidente que en este caso sí para esta cuestión me imagino que si ustedes están de acuerdo en que el tren de alta velocidad

pueda utilizarse también en este caso me imagino que ustedes estarán a favor del tren de alta velocidad son dos preguntas que me gustaría aclarar porque creo

no solo su posicionamiento personal sino su propio posicionamiento como grupo

yo le invito a que se sumen a lo que otros llevamos haciendo

sentarnos a dialogar a acordar y a buscar soluciones para hacer posible que la variante sur ferroviaria sea un proyecto de todos un proyecto
de país que nos ponga de vanguardia en europa muchas gracias eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

estratégica para el futuro de euskadi que lleva muchos años de retraso y que tiene un doble objetivo por un lado mejorar la competitividad del puerto de bilbao facilitando el tráfico de mercancías portuario a través del ferrocarril pasando así gran parte del tráfico de nuestras carreteras hacia el transporte ferroviario

evitando también futuros problemas de saturación de líneas y siendo parte de una futura conexión con la alta velocidad que permitirá conectar el puerto de bilbao en dos anchos en el ancho ibérico hacia la península y en el ancho europeo hacia el corredor ferroviario atlántico y por otro lado eliminar la circulación de esas mercancías

hobetuko du estas serán algunas de las víctimas a las que se refería el señor becerra a los vecinos de santurtzi que van a disponer de una superficie para dedicarla

estas serán las víctimas de esta infraestructura eta gainera gure herriko garapen sozioekonomikoa hobetuko du

la primera entre el túnel del serantes y olabeaga que se ejecutará por el gobierno vasco vía encomienda de gestión

y la segunda entre barakaldo y basauri en la que se realizará el estudio informativo con el mismo objetivo que la primera fase hacer la mejor de las obras para la ciudadanía y para las mercancías que deberá estar finalizado en dos mil diecinueve aunque para ustedes

ya que hace una serie de valoraciones y afirmaciones gratuitas que parecen invalidarlo de inicio y precisamente será en ese estudio informativo donde se podrá estudiar la propuesta

analizando todos los condicionantes técnicos y funcionales a los que se refería el señor damborenea que desconocemos inicialmente

e incluso llegado el momento si ustedes están aquí y en las cortes generales podrán junto a nosotros instar su realización

de la variante sur ferroviaria está publicado en la página web del ministerio de fomento desde noviembre del dos mil quince

y estuvo sometido a información pública y este estudio informativo contiene una información extensa relativa a antecedentes estudio de conexiones cartografía y topografía geología y geotecnia climatología hidrología y drenaje

estructuras túneles y obras subterráneas reposición de servidumbres servicios afectados electrificaciones

planeamiento y ocupaciones análisis multicriterios ocupación planos estructuras etcétera y el estudio de impacto ambiental con todos los contenidos preceptivos falta de información absoluta pues si me lo explica lo podremos entender con estos datos a este respecto un dato importante y positivo que yo creo que todos valoramos positivamente

es que va a ser necesario elaborar un nuevo estudio informativo que según el convenio

por lo tanto se elaborará conjuntamente y se intentarán recoger las alegaciones presentadas al estudio informativo del dos mil quince y no contestadas como bien ha quedado

y entre ellas incluso las presentadas por el propio gobierno vasco que como bien sabe

alegaciones planteadas por otras instituciones y colectivos sociales

un nuevo periodo de información pública donde se podrán hacer nuevas alegaciones y así hacer un proyecto lo más transparente y consensuado posible

sobra decir que además de buscar la mejor alternativa de infraestructura ferroviaria para responder a las necesidades de los tráficos ferroportuarios y a los pueblos de generación de tráficos de mercancía se intentará minimizar todas las afecciones ambientales y sociales de esta infraestructura

parece que coincidimos en lo fundamental lo que usted denominaba en su interpelación los tres pilares de este asunto en primer lugar la necesidad de evitar dentro de lo posible

por los núcleos urbanos residenciales en la margen izquierda y meatzaldea en una primera fase y en bilbao y basauri

en segundo lugar conseguir que el impacto social y ambiental de la infraestructura sea el menor posible de eso se deben encargar los nuevos estudios informativos el de la fase primera y el de la fase

próximamente y en tercer lugar conseguir que la nueva infraestructura sea complementaria con las otras dos infraestructuras que se pretende tener una que ya existe que es la de adif y la otra la y vasca y fíjese que discrepamos aquí parecería una contradicción que algo que plantean ustedes que decía el señor

pero no discrepamos por eso discrepamos únicamente en los tiempos que ustedes plantean de conexión no obstante y a pesar de intentarlo no ha sido posible llegar a un acuerdo con el grupo proponente

porque agradezco su intento y finalmente hemos llegado a una enmienda transaccional entre los grupos nacionalista y socialista que sostienen a este gobierno vasco y el grupo popular que sostiene al gobierno español que son los que han firmado el acuerdo el convenio de encomienda que desbloquea la construcción de esta infraestructura como decía estratégica para euskadi finalizo agradeciendo la predisposición a llegar a un acuerdo del grupo popular y solicitando el apoyo para el resto de grupos a la misma besterik ez eskerrik asko

nik uste dut hori falta dela eta beste guztia da aceptar lo que está hecho

comenzaré respondiendo al señor damborenea porque ha hecho una pregunta muy clara está usted a favor de la variante sur ferroviaria estamos a favor de una variante sur ferroviaria que saque las mercancías

de todos los núcleos urbanos de todos no de algunos sí y de otros no estamos a favor de una variante sur ferroviaria

desde luego el proyecto de dos mil quince no los hace mínimos le respondo evidentemente sacarlo de todos los núcleos posibles como dicen ustedes en su transacción es como decir vamos a tener unos municipios de primera y otros de segunda y eso no es admisible en este país no es admisible

son víctimas los de santurce no la gente de santurce no va a ser víctima

le parece a usted aceptable como exalcalde de un municipio que en basauri

no habrá que dar una solución global y eso es lo que no se plantea hasta ahora porque se plantea una primera fase con unos plazos y una financiación determinada y una segunda fase indeterminada y en el aire evidentemente a eso hay que darle una solución

lo ha dicho el señor andueza acuerdo fruto del diálogo la negociación y el consenso con quién si ha sido entre una consejera

dónde ha habido un consenso con toda la ciudadanía dónde ha habido un consenso con los municipios afectados fíjense el ayuntamiento de barakaldo moción aprobada el veinticinco de mayo

a que antes de presentar cualquier nueva solución o alternativa parcial o definitiva

o sea el ayuntamiento de barakaldo le está pidiendo al departamento de desarrollo económico que se ponga de acuerdo con las asociaciones ecologistas dónde estamos dónde estamos entonces

cuando pedimos en la moción el estudio de viabilidad económica es porque evidentemente lo está demandando la ciudadanía yo coincido en que evidentemente

también es cierto que ahora mismo se transportan el cuatro por ciento de las mercancías por carretera pero de la unión europea nos viene una exigencia hacia el cuarenta por ciento que es lo que se transporta en alemania

qué pasa cuando multiplicamos por diez el número de mercancías que pasan ahora mismo por el centro de santurce sestao barakaldo olabeaga

porque la cuestión no es lo que tenemos ahora sino lo que vamos a tener en el futuro

es oportuna la variante sur ferroviaria otra cosa es que el proyecto actual no lo sea la postura sensata políticamente es la de intentar darle soluciones a la gente que ahora mismo se le está planteando un problema porque evidentemente nuestro grupo

no está a favor del tren de alta velocidad de este proyecto de tren de alta velocidad

de que no se va a construir por desgracia nosotros creemos que sí se va a construir porque se está haciendo

cuando es un tremendo error lo que va a suceder es que vamos a tener túneles que en gipuzkoa van a servir para plantar champiñones o para hacer bodegas de txakoli nada más

que ahora mismo podrá costar la segunda fase de la variante sur ferroviaria porque lo que hay que hacer es racionalizar las infraestructuras

y bueno el señor andueza ha dicho aporten soluciones

a mí y a nuestro grupo no nos importa que no haya acuerdo con el gobierno no nos importa el debate evidentemente sí coincido con la señora ugarte se está dando en términos políticos pero no nos falta valentía política valentía política es ir a donde la gente a la que se le está planteando una espada de damocles ir a donde la gente de gorostiza y decirle con humildad no tenemos la fuerza política para oponernos

a este rodillo no tenemos la fuerza política suficiente y por lo tanto lo que tenemos que hacer

no sufran ustedes las consecuencias que les vienen de este rodillo que como se ha comprobado no tiene ninguna intención de llegar a ningún acuerdo y no por falta de proactividad de la oposición eso es valentía política para nosotros también hubiera sido más sencillo decir no a la variantes sur ferroviaria pero la postura sensata

que con otras cuestiones de alta política gracias eskerrik asko becerra jauna

se va a hacer y como prueba le pongo que en los últimos cuatro años la legislatura pasada la de la crisis económica se invirtió

anteriores de bonanza económica por lo tanto

apostamos o no apostamos pero yo lo que le garantizo es que si gobierna el partido popular

usted nos dice que hay que mejorar las infraestructuras pero yo le tengo que hacer la misma pregunta porque luego

ustedes están a favor de la variante sur o no porque a mí no me ha quedado claro dice que hay que mejorar las infraestructuras pero oiga están a favor o están en contra y

le tengo que decir lo mismo porque me ha dado usted la misma respuesta que cuando hablan de la unión europea

esta es la que hay entonces la variante sur ferroviaria sí pero esta no y cuál plantea usted no no cuál plantea usted claro díganos cuál plantea usted

aquí hay cinco grupos tres estamos a favor nos parece bien ustedes utilizan los argumentos de los que nos parece bien de sacar las mercancías de los núcleos urbanos de favorecer la salida de mercancías del puerto de bilbao el menor impacto posible

pero luego al final parece que no se puede estar a favor de ninguna infraestructura y luego el señor becerra falta de transparencia

se lo acaban de decir hay que contestar las alegaciones

la transacción que hemos hecho hemos puesto con el mayor consenso posible nos lee el acuerdo del ayuntamiento de barakaldo y en qué es contrario

si está recogido que hay que acordar con todo el mundo y buscar el mayor consenso posible ahora también sabemos que el mayor consenso posible no es la unanimidad que nunca

por último y para ir terminando este es un debate político y no técnico

porque señor becerra yo le digo y le he dicho que me parece bien que si se puede utilizar un túnel en vez de dos

si es más barato usted dice que nos ahorramos doscientos millónes oiga a mí me va a parecer fantástico ahora yo solo le digo una cosa

hombre sí es técnico porque los técnicos de adif tendrán que decir si es factible o no es factible yo no lo soy

me entiende a mí todo lo que sea ahorrar dinero a la administración me va a parecer bien

ahí coincido con usted y si hay que hacer un túnel más grande

yo no sé si es viable técnicamente y no sé el costo de las dos cosas

por eso le ha dicho que estábamos de acuerdo con el párrafo de su exposición de motivos pero es que usted plantea que se haga eso porque sí

a lo mejor resulta que no puede es político sí claro es política la decisión

esa es una decisión política y luego tiene su parte técnica porque son los técnicos yo no veo a ningún político trazando líneas por ningún sitio

los que cogen y dicen por dónde y cómo hay que ir y yo con perdón ahí no les voy a discutir ustedes pueden discutir todo lo que quieran pero yo con un técnico pues no le voy a decir por dónde es mejor que vaya la vía o por dónde o si el túnel tiene que ser el doble de grande o no tiene que ser el doble de grande

como no lo sé pues esperaré a que se haga ese estudio

pues se podrán tomar decisiones políticas y este es un proyecto que está en el inicio está en el inicio si van a poder aportar ustedes todo lo que quieran ahora las aportaciones tienen que ser porque se está a favor para mejorar pero las aportaciones para entorpecer o hacerlo inviable

señor becerra ustedes siempre quieren un todo pero para conseguir ese todo

hay que tener soluciones globales yo qué quiere que le diga yo me fio de los informes técnicos los estoy esperando a través de ese convenio vamos a tenerlo vamos a tener posibilidad de tener y de negociar de hablar

y de responder también porque no a las preocupaciones y a las demandas que tengan los diferentes ayuntamientos que como le decía antes canalizan

y hace unos meses la señora tapia aquí presente estuvo reunida con los alcaldes y me imagino que si los alcaldes se lo solicitan se volverá a reunir no creo que tenga ningún problema pero en fin yo como le decía

no parchear soluciones globales no soluciones puntuales

estamos de acuerdo pero no no están de acuerdo o no están de acuerdo luego a partir de ahí si ustedes están de acuerdo

y buscaremos cuál es la solución técnica más viable y si nos ahorramos un dinero muchísimo mejor y si conseguimos que a través de esas soluciones globales las afecciones sean las mínimas posibles o ninguna miel sobre hojuelas

estamos en esa dinámica espero y deseo que ustedes en lo sucesivo también lo estén y así entre todos podamos hacer posible que este proyecto sea una realidad y para terminar con usted dos cositas usted decía que hay que tener valentía pues mire yo le puedo decir

los socialistas vascos hemos tenido la suficiente valentía para defenderlos a capa y espada a pesar de las circunstancias y creo que a buen entendedor

que si algo hemos demostrado en esta tierra durante estos años ha sido precisamente valentía

tenemos un montón de alcaldes que atienden diariamente a las demandas de los ciudadanos no no no haga así que no es ningún titular nosotros estamos con la gente nosotros en esta cuestión llevamos más de diez años

con colectivos de vecinos por tanto no vengan ustedes a darnos aquí ninguna lección de nada porque además de ser

lo que nosotros llevamos haciendo más de treinta años más de treinta años
que en política señores de podemos está todo isiltasuna isiltasuna

por mucho que se empeñen no van a venir aquí a descubrir la polvora porque la pólvora ya está inventada

isiltasuna mesedez la señora ugarte decía que con soluciones pequeñas pueden

es probable que eso por desgracia no sea así decía usted que hay que planificar bien analizar

estamos usted decía que el tren de alta velocidad no se va a hacer cosa que yo creo que no es cierto porque yo estoy firmemente convencido que se va a realizar y usted hablaba de ejemplos que decían que en euskadi tenemos nuestros aeropuertos de castellón particulares en euskadi

le voy a recordar tres uno en epele más de diez millónes invertidos para que la planta no pueda utilizarse ni tan siquiera al cincuenta por ciento descarga ni sé las veces que ustedes lo paralizaron cuando estaban en el gobierno porque eran incapaces

a problemas concretos por no hablar de los más de cuarenta y cinco millónes que le regalaron a una constructora por no hacer nada en fin qué quiere que le diga

el mismo éxito que tuvo como gestora muchas gracias eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

bai eskerrik asko señor becerra claro que hay que dar solución a los vecinos de basauri y de bilbao

está anticipando un problema que además

podrán plantear las iniciativas que quieran y las alegaciones que entiendan oportunas y como hemos dicho se tratará de buscar el mayor consenso posible

la segunda fase entiendo respecto a eh bildu

bueno pues ni en términos técnicos ni en términos políticos nada nuevo bajo el sol salvo las facultades visionarias de la parece que se ha contagiado también del señor becerra siguen ustedes anclados en el pasado siguen ustedes anclados en el no tratando este tema en la pasada legislatura la señora beitialarrangoitia decía estamos en el no

y se vayan incorporando a lo positivo por supuesto que este proyecto no es incompatible con que se mejoren las infraestructuras existentes lo uno no quita lo otro para nosotros ambas mejoras son necesarias respecto a lo que he dicho de la y vasca aclararle que las mercancías de la y vasca no están en duda

un tráfico mixto viajeros y mercancías y

y yo le diría que cual es la propuesta de eh bildu para resolver la problemática de la entrada y salida de mercancías

a la variante sur ferroviaria es fácil pero díganos cuál es su propuesta para resolver esta problemática de la entrada y salida de mercancías del puerto de bilbao cerrar el puerto

cuál es su propuesta para resolver los problemas incomodidades inseguridades

con el tráfico de mercancías por sus núcleos urbanos luego también tendrá ocasión de responderme

no a la variante sur ferroviaria no al tav no a petronor no a la incineradora con sus planteamientos probablemente pudiéramos ser

con menos actividad económica productiva con más desempleo y por tanto con muchos menos ingresos y recursos para el desarrollo de las políticas sociales que anualmente

en este caso lo plantean también sobre la variante sur ferroviaria y el tav

hay que decirles que los demás llevamos trabajando más de treinta años debatiendo y trabajando en esta materia y ustedes ni estaban ni se le esperaba bueno perdón a algunos sí ya que

formaban parte del gobierno que aprobó el plan territorial sectorial ferroviario de euskadi en dos mil cinco y que también aprobó redactó el estudio de alternativas del proyecto

y dos mil siete sabe usted quién ostentaba la consejería de medio ambiente y ordenación del territorio en aquel momento impulsando este proyecto de la variante sur ferroviaria

oponen por lo tanto el debate igual lo tienen que tener primero dentro de su propia casa para aclararse es lo que tiene

fíjense en sus compañeros y muchas veces aliados de elkarrekin podemos

e incluso aún siendo críticos con el tren de alta velocidad en tres de los seis puntos de su proposición no de ley hacen referencia a ella y a su puesta en valor sigan su ejemplo

el gobierno de lakua considera que la propuesta del ministerio de fomento es débil e incompleta ya que esta línea contempla única y exclusivamente el transporte de pasajeros hau ez dut nik asmatu hau

una ruina de proyecto en el sí al superpuerto de pasaia que ha sido otra ruina de proyecto

que tampoco tiene la demanda prevista metroarekin gauza bera ikusiko dugu

ze nik oraindik ez dut ezagutzen un estudio de demanda que ese haya cumplido ez dut ezagutzen

oraindikan ikusteke nago el estudio de demanda de gasco del metro de donostialdea

si va a tener tantos viajeros como decía gasco y sus estudios de demanda ikusiko dugu supersurraren demanda estudioak zer esaten zuen

diez de noviembre el partido popular presentó una iniciativa en relación

una propuesta de reforma de la normativa que regula el sistema de protección

a través de una proposición de ley y también se sustanció una iniciativa legislativa popular con más de cuarenta mil firmas para instar

esta iniciativa presentada como decía el diez de noviembre de dos mil dieciséis se debatió el quince de diciembre y se llegó a un acuerdo entre el resto

un diagnóstico un informe sobre la situación de la rgi nosotros pedíamos expresamente

que regula las ayudas sociales tuvimos oportunidad de abrir el debate también ya la pasada legislatura tuvimos una iniciativa legislativa popular como decía

presentó una proposición de ley como ya he puesto de manifiesto en numerosas ocasiones dichas iniciativas

tanto no tuvo oportunidad de abrirse el debate en esta cámara se aprobó ese acuerdo entre el resto de los grupos en el que el partido popular se abstuvo

que se establecería en el plazo de un mes es decir dicho plazo acaba el treinta y uno dado que la comparecencia también se sustanció el treinta y uno de mayo para establecer el mecanismo más adecuado para facilitar la participación de diferentes agentes e instituciones

el acuerdo demoraba las soluciones en un tema que desde luego entendemos que no podía permitirse el lujo de tener más demoras ya existe un informe diagnóstico avalado por los datos ya existía también un informe técnico también

al que hizo referencia el señor toña la pasada

cuando se habla también de participación de los agentes e instituciones la pregunta era cómo se va a materializar esa participación en ese segundo párrafo al que he hecho referencia que había que establecer el procedimiento en el plazo de un mes ya sabemos cuál es el procedimiento las dos enmiendas presentadas y al final el acuerdo de transacción alcanzado nos habla de constituir

la participación de distintos agentes instituciones en el seno de la comisión de empleo asuntos sociales y juventud

en el último pleno de control a la señora consejera preguntándole expresamente por qué motivos estaba llevando el gobierno vasco o qué motivos estaban llevando mejor dicho al gobierno vasco a retrasar la reforma de la renta de garantía de ingresos después señora consejera

en blanco en esta materia ahora parece ser que el gobierno no quiere asumir su responsabilidad de remitir un proyecto de ley que es lo que corresponde y lo demora en el tiempo

y a la vez se escuda en el parlamento con ese procedimiento que hay que establecer para garantizar la participación de las distintas instituciones agentes

a la mayor brevedad posible el gobierno remita ya un proyecto de ley para empezar a trabajar teníamos dos enmiendas la de eh bildu y podemos hablaba expresamente de constituir una ponencia y la del pnv y el psoe hablaba de que se impulsara la participación de distintos agentes instituciones

colectivos en el seno de la comisión de empleo políticas sociales y juventud bueno nosotros entendemos que esto es una maniobra dilatoria más

distintos colectivos en el informe diagnóstico que se ha elaborado por parte del gobierno vasco que ya fue presentado por la consejera el treinta y uno de mayo es decir la propia consejera en dicha comparecencia nos relató

para elaborar dicho informe habló expresamente de la mesa de diálogo civil de las entidades que forman parte del consejo de administración cáritas

gizartea elkartea aparte de sindicatos comisiones confebask

ha presentado un informe ya especifico sobre esta cuestión en este parlamento al que ustedes ya deberían de estar haciendo caso en algunas de las cuestiones como se señalan en el mismo cuando se hace referencia a la poco coordinación a la existencia de un modelo de atención único en las diferentes oficinas de lanbide

o cuando se hace referencia a la falta de operatividad en todo lo que tiene que ver con la implantación de los soportes informáticos por lo tanto no compartimos dicho planteamiento nosotros desde el grupo popular consideramos que es necesario ya un texto legal sobre el que empezar a trabajar

legislatura se presentó una proposición de ley después de ustedes hurtar el debate a los ciudadanos negando el inicio del debate de esa iniciativa legislativa popular

que el gobierno en cuatro meses trajera una proposición un proyecto de ley

de la normativa una propuesta de reforma de la normativa que regula las ayudas sociales no estamos de acuerdo con el procedimiento planteado por una parte cuando se habla de participación de agente y organismo e instituciones ya han participado en la elaboración de ese informe

relató y explicó de forma muy detallada que habían participado por otra parte ya tenemos una primera participación si ahora

ustedes el acuerdo al que han llegado en el seno de la comisión de empleo asuntos sociales y juventud se tiene

es una segunda participación luego cuando ustedes tengan que remitir el proyecto de ley y de acuerdo al artículo ocho de la ley de elaboración de las leyes

normativo también hay que dar audiencia pública a las organizaciones asociaciones que agrupen a los ciudadanos afectados y que tengan relación con el objeto de la ley es decir estamos ya hablando de tres audiencias la que ustedes ya han dado al elaborar el informe

la que ustedes con la aprobación del acuerdo que ustedes nos proponen hoy aquí van a constituir en el seno de la comisión la tercera en la elaboración

hay un plazo de siete días para que los grupos podamos solicitar comparecencias

puedan aportar algo en relación al proyecto de ley presentado y luego una vez ya sustanciadas las comparecencias si el debate sigue adelante

el debate en el seno de la comisión con la creación de la ponencia correspondiente es decir ustedes con la previsión de que nuevamente se garantice la participación de estos agentes e instituciones están dilatando al final la elaboración de este proyecto

que lo adelantan al primer trimestre en el acuerdo al que han

la legislatura anterior planteamos iniciativas encima de la mesa

planteamos una iniciativa concreta en relación a la modificación

normativa es decir ustedes nos plantean más audiencias donde ya hemos tenido la voz de los ciudadanos y donde encima vamos a tener la voz de los ciudadanos colectivos afectados una vez que ustedes cumplan su responsabilidad hagan frente a su responsabilidad remitiendo ya de una vez por todas ese proyecto

nos da la sensación de que este gobierno está haciendo nuevamente dejación de sus responsabilidades al retrasar la remisión de ese proyecto de ley que no quiere afrontar su responsabilidad

señalar que la pasada legislatura ustedes negaban este problema es decir luego fue a raíz de la evidencia de los datos

realidad y la realidad del funcionamiento de lanbide la realidad de la gestión de las ayudas sociales la realidad de conectar la percepción de estas ayudas a la empleabilidad donde evidentemente se vio que el sistema hacía aguas por todas partes alderdi popularrean pentsatzen dugu

señora consejera se lo diría también el señor lehendakari pero no está en este momento

no nos podemos permitir el lujo de no actuar de que este gobierno siga sin actuar de seguir dejar pasar el tiempo de demorar

y que nos parece muy bien que se oiga la participación de agentes instituciones y colectivos pero es que ya usted los ha tenido en cuenta ya los vamos a tener en cuenta cuando ustedes o mejor dicho ustedes los van a volver a tener en cuenta cuando elaboren el proyecto de ley y luego nuevamente nosotros los vamos a tener en cuenta cuando solicitemos

señora consejera sin más dilación es un texto un texto normativo ustedes además plantearon un informe con una serie de propuestas que entiendo que ustedes las hacen suyas y esas podían plasmar en un texto legal o un texto con rango de ley en un proyecto de ley

era un tema prioritario según las explicaciones que ustedes nos han dado tanto usted en la comparecencia en la que explicó las líneas generales de su departamento o el propio lehendakari en su sesión de investidura

de abordar este tema sin dilación pues nos parece que es bastante tarde la previsión que ustedes contemplaban en el calendario legislativo

que a cuatro o cinco meses de finalizar la legislatura pues

se habían aprobado siete ocho proyecto de ley de los veintisiete si no recuerdo mal que ustedes prometieron se metió el acelerón en los últimos meses de la legislatura y

señorías que ustedes incluso no permitieron ampliación de plazo en dos proyectos de ley las víctimas de motivación política y el proyecto de ley de turismo que además

por otra parte no me valen excusas porque ustedes donde han querido ya han cumplido o han considerado que han cumplido al remitir ya el proyecto de ley de puertos de transporte marítimo ese proyecto de ley ya está en la cámara

se sustanció se dio paso en la pasada mesa y ya por lo tanto inicia su tramitación en el parlamento vasco y ustedes también saben y señora consejera que también se ha aprobado en el pasado consejo de gobierno el proyecto de ley de sostenibilidad energética de las administraciones públicas

y ustedes siguen demorando las soluciones cosa que el partido popular

ustedes demoran las soluciones por una parte abriendo no lo llaman así pero un foro de participación para garantizar la participación de todas las instituciones organismos

tienen la garantía de que van a participar cuando se elabore el proyecto de ley posteriormente en la propia tramitación del proyecto de ley en la cámara y por otra parte lo fían al primer trimestre del dos mil

que mucho me temo que no lo van a cumplir porque además se le solapan todos es decir

ustedes ya para remitir un proyecto de ley en el primer trimestre

las opiniones y todos los documentos e informes preceptivos que requiere un proyecto de ley por lo tanto mucho me temo que si ustedes ya no se han puesto manos a la obra y

para nada cosa que lamentamos profundamente porque este tema exige ya soluciones inmediatas besterik gabe eskerrik asko

jorratu behar dugu hain garrantzitsua den gaia el pasado jueves veintidós de junio ante la presentación de la señora garrido de esta propuesta que nos ha comentado el resto de grupos nos juntamos con una intención honesta de todas y cada una de nosotras de llegar a un acuerdo que nos permitiese

el quince de diciembre un acuerdo de consenso que nos permitiese abordar los objetivos de la reforma de una herramienta tan importante para la ciudadanía como la renta de garantía de ingresos un acuerdo coherente y respetuoso con lo ya acordado en diciembre como no puede ser de otra manera y que además nos permitiese cumplir nuestro compromiso en ese sentido

de no entrar en contenidos para poder seguir precisamente trabajando desde los acuerdos acuerdos imprescindibles para una apuesta seria por la cohesión social

al margen a quien se sitúa al margen de no permitir que el run run del partido popular que pone en cuestión el sistema cale de no permitir que los discursos

de la pobreza o de las personas empobrecidas tengan eco en esta cámara

para poder abordar esta reforma pero y sobre todo un acuerdo que garantice la participación ciudadana ha sido difícil bastante difícil pero lo hemos conseguido

bajo el mandato de la ciudadanía que nos exige que en materias tan fundamentales pongamos por delante mejorar su situación creo que es importante que quede claro que nuestra mano está

tendida para trabajar que con los agentes sociales como no puede ser de otro modo debemos abordar este proceso y por lo tanto debemos construir una reforma alejada de los réditos políticos sin enrocarnos sin enrocarnos ahora

y por lo tanto mejorada para todas ya llegará el momento en el que nos toque

hoy hemos demostrado la pertinencia la posibilidad y la oportunidad también de abordar un debate a la altura de la ciudadanía a la que representamos y en coherencia con los compromisos

eskerrik asko talde guztioi egindako esfortzuagatik proposamen hau onartzeko y señora garrido no sé de qué maniobras habla creo que solo están en su cabeza para nosotras no vale emprender esta reforma de prisa y corriendo no porque no sea urgente o importante sino porque

si corremos y hacemos las cosas unilateralmente en un tipo de propuestas como esta en la que estamos trabajando si no escuchamos a la ciudadanía si no escuchamos

es posible que el producto final que salga sea parcial y por lo tanto no compartido y por lo tanto no

que si no nos movemos va a traer un proyecto propio señora garrido en diciembre se quedó usted sola se quedó su grupo solo usted tendrá que pensar si merece la pena quedarse sola y poner palos en las ruedas en una cuestión que afecta a más

autónoma en eso está claro que todos los colectivos tienen muchísimo que decir está claro que nadie sobra y está claro que la participación ciudadana no es una opción prescindible no es algo de lo que podamos pasar de puntillas no es algo

para nosotras insisto no sobra nadie y es fundamental escuchar a todo el mundo pero no le voy a dar

nosotras seguimos con las manos tendidas tenemos propuestas tenemos muchas pese a que haya quien diga

con el máximo consenso aquí dentro pero y de una forma imprescindible con la ciudadanía con la que ha estado dentro en lo que va de proceso y con la que se ha quedado fuera también

también desde luego y con el marco de que ni un paso atrás en el derecho a la garantía de ingresos besterik gabe mila esker

para modificar la ley de garantía de ingresos y de inclusión social de una manera participativa y absolutamente responsable porque este grupo en muchas ocasiones se ha manifestado y ha dicho y ha planteado la necesidad de modificar

pero no porque creamos que el sistema no sea válido sino porque es evidente que desde que se creó desde que se creó han cambiado muchas cosas desde la aprobación de esta normativa vivimos en un país donde la realidad socioeconómica es diferente ha cambiado sustancialmente nuestro país soporta más pobreza más pobreza cronificada más desigualdades una grave fractura social y es nuestra responsabilidad

a esas nuevas necesidades que actualmente no están cubiertas y también es necesaria la modificación y trabajar porque el sistema por diferentes motivos se ha visto desprestigiado y cuestionado y es por eso que además de modificar la normativa sin duda y por desgracia también nos va a tocar hacer mucha pero mucha

que somos a los que nos toca legislar pero hagamos partícipes también al resto de agentes imprescindibles en este proceso

muchas gracias presidenta el grupo socialista celebra que en esta cámara haya un amplio consenso para abordar con plazos

con mucha voluntad una reforma del sistema vasco de protección social para reforzarlo y atender a quienes lo necesitan y por distintas razones

es compromiso de mi partido y del partido nacionalista vasco

mes de noviembre que esta reforma se abordara desde un diagnóstico hecho por especialistas y que se trasladara a esta cámara en el primer semestre de la legislatura

y se aprobó la enmienda transaccional el quince de diciembre del año pasado y que para el mes de mayo se remitiera este diagnóstico con propuestas sobre las que realizar las aportaciones ese compromiso y esa voluntad se han cumplido y con el informe presentado

el treinta y uno de mayo en la comisión de empleo y políticas sociales se cumple eso y ese compromiso y esa voluntad se han mantenido por parte de los grupos que suscribimos

que al margen de las legítimas diferencias que se puedan mantener sobre las propuestas nos hemos empeñado en buscar una fórmula para encauzar

es una de las mejores inversiones que los vascos hemos sabido hacer como país para garantizar la cohesión social con el tiempo se pueden mostrar

mejorar pero lo más importante es que este parlamento queremos hacerlo más fuerte para que siga siendo una referencia en todo nuestro entorno los socialistas hemos participado en todos y cada uno de los momentos en que ha habido que tomar decisiones sobre este sistema desde hace treinta años

estando en el gobierno y lo hemos hecho estando en la oposición incluso manteniendo serias diferencias con el ejecutivo de turno en otras cuestiones pero siempre nos hemos esforzado en perfeccionar el modelo ahora también lo queremos hacer y esperamos

y es en lo que nos volcaremos en los próximos meses consideramos que la enmienda transaccional que hoy vamos a aprobar con el acuerdo entre el partido nacionalista vasco el partido socialista vasco

bildu da un paso para seguir avanzando en esta línea y poder acometer en breve la reforma de la renta de garantía de ingresos y los socialistas

de que el grupo popular quiera trabajar de una vez en una reforma serena sosegada y honesta de la renta de garantía de ingresos discursos electoralistas y que empiecen a pensar en trabajar con todos los grupos para mejorar la normativa actualmente vigente en beneficio de todos

muy claro creo que no hay nada más que decir nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak

por lo tanto empecinarse en lo que podía haber sido y no fue no tiene ningún sentido señora garrido estamos

con las peticiones realizadas por el parlamento y además lo hace en el plazo otorgado al efecto ez gaude batere ados alderdi popularrak

el gobierno ha cumplido con la petición realizada por el parlamento además de presentar el documento de bases para la mejora de la renta de garantía de ingresos se le instó a liderar el proceso de modificación en la comisión donde vino a dar las explicaciones pertinentes esa petición fue realizada por la portavoz de bildu la señora kortajarena y compartida por elkarrekin podemos

presentamos la enmienda a la totalidad con el partido socialista en la que pedíamos al gobierno que presentara en el primer trimestre del dos mil dieciocho el proyecto de ley de modificación de la ley dieciocho barra dos mil ocho para la garantía de ingresos y la inclusión social señora garrido usted tiene la suficiente

lo que cuesta un proceso legislativo dentro del propio gobierno y a pesar de que estaba contemplado para el segundo semestre del dos mil dieciocho el gobierno se ha comprometido

esta enmienda a la totalidad que presentamos el partido socialista y el partido nacionalista vasco que salvo el punto tercero ha sido recogida como enmienda de transacción

eta lan dezagun nos marcamos como objetivo conseguir los máximos consensos para la modificación de la normativa reguladora de la renta de garantía de ingresos buscamos alcanzar acuerdos en aras a mejorar dicha ley

sin olvidarnos que hemos de ser responsables y capaces de responder a las necesidades actuales futuras por lo que hemos de conseguir un sistema mejorado y sostenible en el tiempo para lo cual es necesaria e imprescindible la colaboración de todos los grupos agentes asociaciones e instituciones que quieran aportar besterik ez mila

gráfica en mi primera exposición pero sí me gustaría aprovechar este segundo turno para dar respuesta a alguna de las cuestiones que se han argumentado

de que dónde están las maniobras dilatorias yo me remito a los hechos claro cuando dice usted que no sobra nadie me imagino que se

las cuarenta mil firmas de la iniciativa legislativa popular digo por aquellos de que ustedes consideran que están tan

que la pasada legislatura pues no se tomara en consideración ni siquiera la ilp suscrita por más

a la voz de los ciudadanos y ciudadanas vascas representadas

esa iniciativa legislativa popular pero aparte es que el procedimiento ya garantiza

escuchar a los colectivos a las instituciones a los agentes cuando se elabora un proyecto de ley yo sé que ustedes son nuevos en este parlamento pero hay una ley expresamente que regula cómo se deben de tramitar

el gobierno está obligado a dar audiencia a todos aquellos colectivos que tienen o que les afecta mejor dicho el texto normativo y que además se regulan cuestiones que les afectan o que son objeto de la regulación de ese texto

un proyecto de ley y se ha aprobado otro en consejo de gobierno es decir en esos temas el gobierno

darse mucha prisa la pregunta es por qué el gobierno dilata la remisión de algunos proyectos de ley a esta cámara y otros no pero bueno parece ser que uno ya lo ha remitido y otro se ha aprobado en consejo de gobierno bueno pues esas áreas en concreto han tenido más suerte que esta área que yo pensaba que era prioritaria y este tema en concreto para este gobierno la audiencia a la hora de valorar el proyecto de ley pero es que luego los grupos podemos solicitar comparecencias

todas esas sugerencias o aportaciones que se hayan hecho por parte de los colectivos a los que se les audiencia es decir es que corremos el riesgo de que audiencia tras audiencia porque ya hemos tenido una primera audiencia para elaborar este informe diagnóstico presentado en comisión

van a ser cuatro audiencias y por otra parte a mí se me solapan

el primer párrafo con el segundo porque si ustedes en el segundo adelantan la remisión del proyecto de ley al primer trimestre del dos mil dieciocho pero en este último cuatrimestre se tiene que dar audiencia

no sé para qué ustedes les dan esa audiencia si luego eso va a ser inviable incorporarlo a un proyecto de ley

si se quiere remitir en ese primer trimestre por lo tanto quiero decir que este primer y segundo párrafo es absolutamente contradictorio

ya tenía que estar elaborándolo y dando audiencia y también realizando todos esos informes por parte de los organismos e instituciones que son preceptivas en incorporar todos los informes a un proyecto de ley claro es que el acuerdo de hace seis meses señora blanco a este grupo le pareció insuficiente por eso nos abstuvimos es que nosotros

planteábamos una modificación de la normativa es que va a hacer casi un año porque el tiempo

nosotros lo único que pedimos es que el gobierno trabaje y asuma su responsabilidad con la remisión de un proyecto de ley ya

le he dicho señora arregi

el tema de que se contradice claramente el punto

es mejorar no solo mejorar es que subsanar las deficiencias que ya se han detectado en el sistema que sea justo que sea sostenible

de los sistemas más avanzados del resto de españa y de europa sí pero

se habilitan quinientos millónes de euros todos los años creo que

conlleva el que el sistema no tenga déficits se subsanen las deficiencias nosotros vamos a seguir trabajando señora sánchez no se preocupe igual que lo hicimos cuando en el dos mil uno acordamos una propuesta de modificación de la ley en la que ustedes

que el partido nacionalista votó en contra como el que por rechazar un trabajo

se suspendiera la rgi es que esas fueron propuestas del partido popular y por trabajar en ese entonces pues se pudieron incorporar en la modificación de la ley en ese momento pactadas con ustedes

señora presidenta señorías

es que ustedes tengan mucha suerte pero me da la sensación de que hoy nuevamente

a la labor que nos corresponde y sobre todo a la responsabilidad que todos nosotros hemos adquirido con los ciudadanos en la resolución de los problemas y de las preocupaciones que tienen y desde luego este es un problema que preocupa claramente a los ciudadanos y no hay más que ver los resultados en

aunque no parece que le interese mucho piense de verdad piense

por qué sigue sola ahora y qué es lo que aporta eso a los intereses de la gente a la que usted

de hecho presentó un calendario legislativo y va adelantar hay un compromiso para presentarlo en el primer trimestre en vez de

el compromiso de traer ese proyecto de ley aquí que esperemos poder contar con esa preocupación

e ideas que tiene para mejorar la ley esperemos que las aporte cuando trabajemos al respecto besterik ez mila esker

para arrancar con este punto quiero poner en conexión dos informaciones una primera nos habla de que en holanda

internos la otra se refiere a una información remitida

el ministerio del interior de la cual se extrae que entre el año dos mil seis y el dos mil quince

han muerto en prisión la primera pregunta que les querría trasladar es cuál es el modelo de estado cual es el modelo penitenciario

atraídos hacia dónde miramos si hacia holanda donde cierran cárceles o hacia españa donde

sigo con esta conexión entre hernani y maastricht en el sur de holanda por poner un ejemplo hay mil doscientos kilómetros solo un poco más

y almería allí en almería

e incurable uveítis aguda bilateral y espondilitis anquilosante enfermedad de gravedad incurable y dispersión dos variables mortales por distancia

civilizado que vela por los derechos de la persona presa sin embargo está en españa y lamentablemente tiene boletos de engrosar ese listado del ministerio de interior de personas muertas

vuelvo a preguntar con qué modelo de estado con qué actitud con qué modelo penitenciario nos sentimos más reflejados aquí nuestra respuesta es evidente está clara

duintasunez baretzeko eta ahal den neurrian leuntzeko eskubidea en esa cadena de bloqueos el último eslabón ha sido el de la instrucción tres barra dos mil diecisiete de dirección de instituciones penitenciarias según esta instrucción solo

patente para la vida del interno no parece que es muy certera esa acreditación no parece que se acierta a la vista de esas mil ochocientos catorce muertes que reconoce el ministerio de interior

tranquilos ante semejantes cifras no podemos permanecer impasibles ante estos datos y ante esta instrucción que en cierta manera nos condena a reproducirlos más el propio ministro de interior se atrevía a dar un último a esta ruleta rusa el plazo para la excarcelación será de dos

presuntamente los médicos tendrían la capacidad de establecer semejante término pero ya vemos que no es así dos médicos nos lo explicaron dos médicas nos lo explicaron en otra comparecencia celebrada en la propia comisión de derechos humanos

más irrebatible que he podido ver nahia y esti gorostiaga medicas del servicio vasco de salud nos lo explicaron que no hay médico que pueda constatar semejante término de dos meses

al código deontológico más elemental no se puede concretar el plazo de vida de un paciente con semejante precisión esta instrucción y la posterior interpretación

pervierten la propia función del facultativo pero también

que no está hecha para mantener en prisión al preso enfermo cueste lo que cueste sino precisamente para darle la oportunidad de ser puesto en libertad de recibir los cuidados paliativos

de ofrecerle calidad de vida de ofrecerle si es posible que tenga la expectativa de alargar su vida lo más posible porque cualquier otra cosa

galdegiteko tal vez el texto que hoy presentamos

tal vez no es estrictamente el texto que ninguno de los grupos que lo estamos sosteniendo querríamos apoyar pero quiero concederle el valor al acuerdo porque en una cuestión que parece complicada y que resolvemos ahora

de respeto a la dignidad de la persona y de respeto también a lo que la ley

espero además que favorezca que nos podamos poner de acuerdo también

sailburuok compañeros parlamentarios compañeras parlamentarias hemos leído con atención la iniciativa del parlamentario

sobre el problema de los presos enfermos con problemas graves o terminales

apoyamos la moción apoyamos la proposición no de ley junto con el partido nacionalista vasco y los socialistas vascos ha sido una ingeniería de síntesis de proposición no de ley que hay que agradecer a los que lo han

elkarrekin podemos cuando habla de presos enfermos no habla de presos con más o menos derechos no habla de presos

que están en las cárceles hablamos por ejemplo del último preso vasco que conocemos que ha muerto en la cárcel

dieciocho años en primer grado en veintidós metros cuadrados aislado

declaraciones institucionales no hubo muchas movilizaciones sociales

de dignidad es un problema de cualificar nuestra democracia es un problema de que a la cárcel no mandas a la gente a morir no mandas a la gente a que cronifique su propio delito

drogodependiente en la cárcel no mandas a la gente a que cronifique sus enfermedades

de acuerdo con las sentencias judiciales en marcha y además se aplica la ley hemos conocido

los informes médicos de algunos de los presos enfermos de los que ha hecho referencia el parlamentario julen arzuaga como ibon iparragirre hemos trabajado con las doctoras nahia aia

entre otras y hemos visto los informes periciales los informes médicos

en el parlamento y fuera del parlamento somos de los colectivos médicos yo mismo he sido propagandista de la firma junto con más de trescientos médicos de euskadi

la indignidad de la situación los médicos no somos carceleros y los médicos tenemos responsabilidades éticas de carácter humanitario con los presos y presas gravemente enfermos y terminales

los documentos jurídicos internacionales los documentos jurídicos del estado español y hemos leído las propuestas de varias organizaciones internacionales

la inseguridad jurídica y la falta de aplicación del propio ordenamiento jurídico internacional en estos asuntos no se puede agravar

con temas como el sida con temas como las drogodependencias con el tema como las enfermedades crónicas no

tengamos o no tengamos la sanidad penitenciaria transferida la calidad democrática de nuestro gobierno y de nuestro país tiene que ver

la constitución del setenta y ocho el código penal en sus artículos ochenta punto cuatro noventa y uno punto uno noventa y uno punto tres

son explícitos y exhaustivos en definir la reasignación de tercer grado la reducción de penas y la excarcelación en casos de enfermedad grave terminal irreversible nuestro ministro de interior no está bien informado

para organizar los derechos civiles es imposible

y no compartimos estrategias de venganza para organizar la gestión del marco penitenciario de la mayoría de los reclusos y reclusas decía

hasta dos mil reclusos y reclusas han muerto son datos oficiales

qué pasa no hay médicos

no hay conciencia democrática no hay calidad no debemos defender la dignidad humana la condición humana de nuestra gente

en función de qué nosotros tenemos prestigio y calidad democrática como parlamentarios como gobierno en función de nuestra capacidad

sea sara o sean otros presos y presas no podemos por menos que

para mejorar ostensiblemente las condiciones de salud

puede ser una imagen puede ser un ejemplo para otras comunidades autónomas y para el propio gobierno español nosotros consideramos que

son elementos que van de la mano no solamente porque lo diga

sino porque es parte del mismo juego dar calidad a la vida

basta ya de vulneración sistemática de derechos humanos basta ya de vulneración de la propia legalidad basta ya de no ejercer unos principios mínimos de ética como transversal de la gestión de prisiones de la gestión de las condiciones de los presos y presas apostar por el ojo por ojo

que pueden dinamitar los procesos de reconstrucción social que puede dinamitar los procesos de paz en marcha

otros lo destruyen por otra basta ya de que

rompan los procesos de cohesión social y basta ya de que los procesos de venganza rompan la necesaria reconciliación que estamos en juego en este país en estos momentos que hayamos llegado a un acuerdo cuatro grupos parlamentarios en esta proposición no de ley es

el inicio bajo el punto de vista político social y jurídico de otra forma de pensar y de otra forma de gestión y nos preparamos para la transferencia de prisiones sin duda no estamos a favor bajo ningún punto de vista del ensañamiento con las personas presas no estamos a favor

no estamos a favor de incumplir la ley no estamos a favor

antisociales y fuera del marco de los estados de derecho fuera del marco de los estados modernos donde valores de derechos civiles y derechos sociales tienen que ser

estamos a favor de derogar una estúpida instrucción que es la tres barra dos mil diecisiete de instituciones penitenciarias

a las víctimas a todas las víctimas hay que escucharlas hay que respetarlas hay que compartir relatos pero las víctimas no toman decisiones políticas

las víctimas con su dolor con su reconocimiento con su capacidad organizativa con su capacidad de exigir reparación tienen un trabajo interesantísimo que nosotros y nosotras apoyamos

no toman decisiones políticas no podemos estar de acuerdo pues para acabar con una política penitenciaria transferida o no transferida que no busque procesos de consensos sociales y políticos

en clave de cultura de derechos la relación con nuestros presos y presas más con nuestros presos y presas enfermos más con nuestros presos

enfermos graves no hay excepcionalidad legal sea de tipo que sea

sean presos y presas comunes y corrientes

porque tienen derechos independientemente del delito que han cometido ese es el ordenamiento jurídico internacional

esto no es un tema de opinión de opinión en el bar en la calle o en el parlamento

no puede haber procesos de reinserción social no puede haber procesos

el penado o la víctima el preso cumpla su delito sin que tengamos en cuenta esta cultura en la forma de organizar

a todas y a todos el debate que hoy nos ocupa entiendo que no debería ser ni tergiversado ni manipulado ni decantado

y que ya se ha hecho alusión no hablamos de lados ni de partes sino del pronunciamiento del parlamento vasco en favor del cumplimiento de unos derechos

o con padecimiento incurables el grupo socialista se trata de la protección y la garantía de los derechos está en el cumplimiento de la ley y en que el cumplimiento de la ley es el mayor y el mejor ejercicio de defensa de un estado democrático

tanto el que reconoce el derecho a la protección de la salud que

y tutela como el que reconoce que toda persona condenada a pena de prisión

la prohibición de penas inhumanas y degradantes partiendo de esa base no podemos sino compartir

en cuanto a la excarcelación de esas personas presas gravemente enfermas o con padecimientos incurables aquellas personas que confiamos en la ley

como uno de los mejores instrumentos de defensa de los derechos humanos y del propio funcionamiento democrático no deberíamos de aceptar nunca sobre su aplicación excepciones ni decisiones arbitrarias o irrazonadas al respecto nunca porque eso es lo que marca la diferencia de un estado democrático

y nadie que conozca además su base constitucional y legal como nadie debe

no solo al legislador sino también al intérprete y al ejecutor de las medidas y de las normas la concesión de estos beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las penas privativas de prisión enlaza directamente con bienes y derechos constitucionalmente consagrados

de forma necesaria la no dilatación hasta las fases terminales de la enfermedad no se trata de ser más flojos ni más duros ni más firmes

sino de constatar como hace la legislación cuando prevé estos supuestos que una pena de prisión sí se le acumula el padecimiento de una enfermedad grave incurable puede convertirse en una pena inhumana por cruel

y los tribunales internacionales pero también los nacionales tanto el tribunal supremo y el tribunal constitucional así lo han dicho hay quienes establecen los límites al determinar que la legislación está pensada para enfermos terminales

no debe ser interpretado tan restrictivamente que pueda llegar a confundirse con un enfermo agónico o cercano a la muerte ni la letra ni el espíritu ni la finalidad ni la intención de las normas era esa tampoco podemos hacerlo a la hora de interpretarla o aplicarla

los tribunales nacionales e internacionales no exigen la existencia de un peligro inminente o inmediato de muerte como tampoco significa que cualquier dolencia

entre uno y otro está la interpretación que exige la ley y los tribunales insisto

pero permite un tratamiento médico más humanitario y en condiciones mejores para su evolución y tratamiento de los padecimientos que conllevan dichas enfermedades

que las socialistas pedimos que no es otra que la del espíritu de estas normas que han confirmado nuestros tribunales por eso pedimos al ministerio de interior que reconsidere su posición y apoye esta aplicación que estoy seguro

de la vida no se mide en meses ni en dos ni en seis ni en días ni en momentos no se extiende o se acorta el periodo

al menos en cuanto a su duración desde una perspectiva ética y médica

sino también cualquiera que sea este a las condiciones de esa supervivencia de esa existencia aunque no sea previsible un fallecimiento inminente o inmediato si la situación es extrema

tratamiento y solución a las mismas con las decisiones que prevé la legislación nacional

el estado de derecho como hemos hecho siempre los socialistas vascos porque creemos firmemente en el mismo y en toda la estructura democrática defendemos pues lo que hicimos ayer y hacemos hoy y

no nos lo permitieran y nos persiguieran para silenciarlos defendemos hoy ese estado de derecho y con ello esos derechos que asisten por razones humanitarias

incurables es importante entonces destacar que las nuevas realidades también ahora el nuevo tiempo obligan a nuevas políticas y estamos obligadas a realizarlas políticas que por otro lado no nos las vamos a inventar están previstas y son conformes a la legalidad vigente eta hace más de cinco años que no está no se la espera

y de ello solo esperamos su disolución pero es una decisión que solamente le pertenece a ella y a ella de exigírsele el grupo socialista

además en esta materia como si todo siguiera igual como si nada hubiera pasado

no podemos compartirlo porque era muy doloroso para la sociedad vasca y para muchas de las personas presentes aquí cuando lo estaba por eso

siendo impecables y escrupulosos en su garantía y en el respeto de los derechos fundamentales que ese estado de derecho protege y que también es el de las personas

e incurables cumplir la ley señorías nunca puede suponer nunca es una rendición ni una claudicación

cumplir la ley es lo que marca la diferencia y respetar los derechos humanos

defender los derechos humanos por encima de todas las cosas siempre defender los derechos humanos rafi también de las de aquellas personas que los vulneraron yo suelo decir que injustamente pero compartimos que estas decisiones

sobre la mesa de este parlamento en numerosas ocasiones digo desgraciadamente porque constatamos nuevamente que se desoye cualquier reclamación que suponga una mínima mejoría

hasta hoy no se ha avanzado no hemos visto respuesta desde un punto de vista humanitario hoy hemos podido conocer

una gota de agua en un desierto aunque desearíamos que fuese la apertura de un grifo

nos conduzca a una nueva política penitenciaria más humana y no vamos a cejar en ese empeño vamos a repetir y reiterar

es factible y es perfectamente legal los derechos humanos

los derechos humanos son un compromiso completo o se está con todos o no se está no caben excepciones o divisiones tampoco interpretaciones interesadas y arbitrarias

todos los derechos humanos para todas las personas en todos los lugares este es el camino y esta es la propuesta que hoy reiteramos y el derecho a la salud es un derecho universal y así está recogido en la declaración universal de los derechos humanos

independientemente de la gravedad de los delitos que hayan cometido deberán cumplir su pena sí pero nos corresponde

dignas es nuestra responsabilidad una atención digna y humana universal para todas las personas lo reclamamos por un principio básico de humanidad

las cárceles no son un compartimento estanco de los derechos humanos en las cárceles no se vulneran los derechos de las personas no se deben vulnerar los derechos de las personas humanidad significa justicia significa respeto a los derechos humanos

pero desde el respeto a estos derechos ni menos ni más las personas presos tienen sus derechos y no podemos ni debemos conculcarlos nunca y menos

de táctica o de cálculo a todos quienes proclaman y reclaman el cumplimiento de la ley hoy es un buen día para recordarles que la ley precisamente la ley penitenciaria está para cumplirse hoy tratamos una cuestión delicada

y contamos con una legislación que contempla y posibilita su excarcelación esta previsión

está recogida tanto en el código penal como en el reglamento penitenciario es ley apliquemos por tanto la ley

solicitando un cambio en la política penitenciaria un cambio sustentado en un principio constitucional la reinserción

ha presentado programas políticas y propuestas específicas que favorezcan el acercamiento y la búsqueda de soluciones humanitarias y legales a la situación de los reclusos enfermos los programas hitzeman o zuzen bidean son aplicables

es posible por tanto es factible y es legal estos programas responden a un compromiso firme son conocidos

tanto al gobierno español de primera mano como también a los presos de eta

han enviado la modificación de la actual política penitenciaria

el fin de las medidas excepcionales es posible es razonable y es necesario es conveniente porque además estamos construyendo la convivencia futura

porque hemos consensuado y defendemos un texto común que plantea un compromiso con los derechos humanos con todos los derechos comenzando por el más elemental que es el derecho a la vida

gracias señora presidenta buenas tardes a todos en primer lugar me voy a referir a la proposición no de ley original

la réplica me referiré a la enmienda ayer

de eta en esta cámara hoy volvemos a hacerlo no es la primera vez tampoco en esta legislatura lo hicimos

y tampoco es nuevo en esta cámara lo hemos hecho en otras ocasiones hablar de presos enfermos y voy a empezar de la misma manera que empecé la última vez que tratamos este asunto diciendo

colocarnos en la ceremonia de la confusión aunque me vuelva a criticar por utilizar este término manipula

intencionadamente la verdad y algunos caen en esa manipulación y en ese falseamiento en la iniciativa

no está hablando de presos vascos está hablando de los presos de eta habla de las enfermedades de los presos

porque ocultan los tratamientos ocultan que hay intervenciones ocultan la atención que reciben hace referencia en la iniciativa y aquí también

el reconocimiento al derecho a la salud de cualquier preso derecho que no está en duda

porque nuestra legislación reconoce el derecho a la salud de los penados y la normativa penitenciaria recoge prestaciones sanitarias para los internos no

concretamente porque aquí se habla de la legislación pero nadie menciona nuestra legislación que para algunos parece que estuviesemos en un estado bananero

que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando en todo caso la personalidad humana de los reclusos

de los mismos y siendo la administración penitenciaria la encargada de velar por la vida la integridad y la salud de los internos para hacer efectivo este mandato legislativo

se les facilita una atención sanitaria de carácter integral que incluye medidas tendentes a la prevención la curación y rehabilitación de los internos equivalente a la dispensada al conjunto de la población cuanta con recursos y profesionales propios la administración penitenciaria con ellos no es posible esta atención cuenta con el acceso a la atención especializada que dispensa el sistema nacional de salud los reclusos todos los reclusos todos los reclusos vascos todos los reclusos por terrorismo de eta que son los que a usted le interesa señor arzuaga tienen asegurado su derecho a la salud a través de los medios facilitados por la sanidad penitenciaria y son sometidos a controles médicos pertinentes como le digo todos

me refería si se valora que su evolución requiere el inicio de un procedimiento para la excarcelación anticipada se inicia ese procedimiento y decide la autoridad judicial

cuando habla de excarcelación pero no habla de los requisitos exigidos para esa excarcelación porque la legislación penitenciaria

esta legislación establece que por razones de dignidad y humanidad sí contemplado en nuestra legislación y con la que este grupo está de acuerdo por razones de dignidad y humanidad

con padecimientos incurables se les puede conceder la suspensión de la condena y el acceso a la libertad condicional de forma anticipada

dos supuestos claramente diferenciados uno el previsto en el artículo noventa y uno párrafo tercero del código penal

y cuando existe un peligro patente para la vida del recluso apreciado por los servicios médicos que lo atienden y los médicos forenses en este caso

sin más requisito que pedir al centro penitenciario un pronóstico de peligrosidad todo ello aplicando criterios médicos y en aplicación de lo dispuesto como se ha dicho aquí por el artículo ciento cuatro punto cuatro del reglamento penitenciario

se pida la aplicación de este reglamento ya se aplica de este artículo perdón el otro supuesto porque como he dicho existen dos supuestos el otro supuesto es el previsto en el artículo

grave pero no exista un peligro patente para la vida en este caso para la excarcelación anticipada es preciso haber cumplido las tres cuartas partes de la condena las dos terceras o la mitad de la condena para ello el penado ha de ser clasificado y progresado a tercer grado y que se haya observado buena conducta con relación a los penados condenados por delitos de terrorismo o de pertenencia a organización criminal deben haber cumplido la mitad

renunciar y abandonar los fines y medios terroristas pedir perdón a las víctimas y colaborar con las autoridades por tanto

enfermos se hace se realiza como decía bajo estrictos criterios médicos

y en última instancia el juez de vigilancia penitenciaria es quien tiene la decisión final adopten sus decisiones el ministro del interior cuando fue interpelado

en el congreso de los diputados señaló que no existe en este momento en españa ningún preso que reúna los requisitos

lo ha sido como bien se ha dicho aquí señaló que en ninguno de los casos se ha detectado ese grado de enfermedad que parece tengan la suficiente entidad para poner en marcha el mecanismo de la anticipación

porque los presos de eta deben cumplir también la normativa señorías deben cumplir con los requisitos que la ley exige para ser excarcelados

están pidiendo que determinados requisitos no se cumplan para los miembros de la banda terrorista eta pretenden una excarcelación

señalar que lo que pretende es regular y aclarar las excarcelaciones por enfermedad conseguir una gestión homogénea en los procesos administrativos

del código penal proporcionando indicaciones claras a los servicios sanitarios sobre la forma de proceder como digo su finalidad es una aplicación homogénea están sujetas estas instrucciones a la jerarquía normativa y por lo tanto no es cierto como algunos han dicho que sean contrarios a la normativa penitenciaria porque si lo fueran no podrían

son los encargados de decidir sobre este tipo de excarcelaciones y la administración penitenciaria no está legitimada para impugnar ninguna de las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria pero como le decía señor arzuaga pretende negar todo lo que yo he relatado porque su objetivo es el de siempre es victimizar a determinado colectivo de presos

de forma injusta ante un estado que usted como digo ha retratado aquí

como un estado de derecho bananero en el que los derechos de las personas los derechos humanos no se respetan todo lo relacionado

porque como digo quiere mostrarlos como víctimas de un sistema de un estado que oprime y no respeta sus derechos por ello queremos reiterar nuevamente que nuestro estado de derecho rige

porque aquí parece que todos los grupos han puesto en duda que nuestra legislación penitenciaria rija el principio humanitario y no es así y no es una legislación que haya inventado o que haya instaurado el gobierno del partido popular

lleva en vigor todo el periodo democrático y respeta el principio inmunitario en cualquier circunstancia ha dado muestras de magnanimidad y de generosidad

legislación la integridad y la dignidad de la persona el principio de la humanidad a cualquier otro tipo

recordamos casos muy concretos en los que el estado de derecho

a pesar de decisiones muy controvertidas a pesar de decisiones muy dolorosas también ha aplicado de forma estricta los parámetros legales por lo tanto no podemos permitir poner en cuestión señorías las garantías que ofrece

y sobre todo y voy terminando señora presidenta en materia de derechos humanos

ni media lección a quien todavía a día de hoy sigue sin condenar el trato desde luego nada humanitario que eta infringió a sus víctimas y a toda la sociedad vasca y la situación penitenciaria

depende de los presos de eta miren ustedes hacia dentro

asuman su responsabilidad ustedes condenen el trato poco humanitario que eta infringió y entonces podrán dar lecciones a los demás hasta entonces ninguna

usted señora llanos nos dice que están perfectamente tratados todos los presos están perfectamente asistidos ahora mismo en la bancada de memoria hacíamos un pequeño ejercicio de recordar aquellos presos vascos que

fruto de la desasistencia y de la falta de tratamiento joseba asensio

el último hace pocos años que en esta misma sede expliqué qué caso estábamos tratando

no creo que tenga la capacidad de manipular y de tergiversar un al cual hemos llegado cuatro grupos la mayoría aplastante de esta sala y además con un texto en el que nos vemos reflejados cierto que cada uno de los grupos puede en torno a este texto hacer sus propias valoraciones pero un texto en el cual realmente nos sentimos reflejados

el pp qué problema tiene de estos cuatro puntos en términos de legalidad en términos de dignidad humana en términos de derecho a ponerse de acuerdo a poder apoyar al menos alguno de estos cuatro puntos algunos más

exigencia mayor pero otros con menos más laxos que yo creo que

partido si al menos y creo que esa es la cuestión tendría voluntad para ello me habla de requisitos para la excarcelación me da una lección ahí sí una lección de lo que dice la ley pero lo que pasa es que precisamente lo que sucede es que la interpretación de esta ley es lo nefasto

pervierte esta normativa y le recuerdo lo que dijo además

debe tener un informe motivado y certificado por profesionales médicos no obedeciendo en ningún caso a criterios subjetivos lo que pasa es

el criterio subjetivo que es la certeza de fallecimiento en un plazo inferior a dos meses el informe médico está razonado es objetivo

por qué no dos años por qué no dos semanas si la intención suya es precisamente eso el cebarse con el preso

desarrollar una actitud vengativa no es absolutamente irracional no es absolutamente arbitrario

estos dos meses de plazo tal vez el señor uria puede tener más suerte a la hora de explicar si es para eso para lo que están los facultativos médicos si es para eso para lo que están los médicos si un médico puede establecer con semejante exactitud

si no lo hacen además si pueden tener una actitud rebelde precisamente con instituciones penitenciarias porque les están solicitando que haga algo de lo cual so humanamente incapaces de hacer y muchos más aún profesionalmente

pero es que sucede algo más que su portavoz en la comisión de derechos humanos la señora bengoechea se rindió a la evidencia y ella misma formuló que el señor ministro se podía haber mantenido callado su ministro

se podía haber mantenido callado a la hora de establecer semejante término vuelvo a decir absolutamente irracional absolutamente

dos variables precisamente de la arbitrariedad primero

penitenciaria segundo política de dispersión un coctel mortal separación del entorno del

del entorno sanitario considero que es importantísima la competencia transferida de salud penitenciaria

de estas tres provincias pero de qué les sirve a los presos dispersados esta

cómo pueden beneficiarse de ellas si precisamente están en prisiones en la cuales no tiene esta competencia en las cuales se están tratando a los presos absolutamente más lesiva que a cualquier otra persona desde un punto de vista del principio de igualdad

ha tenido la oportunidad de haber sido diagnosticado en el servicio vasco de salud estuvo aquí y podía haber sido evaluado en osakidetza sin embargo alguien tomó una decisión de

a alcalá de vuelta sin que pudiera recibir un examen en

yo creo que ustedes se encuentran en una soledad que es escandalosa

el resto hemos decidido moverse movernos hemos decidido avanzar eskertu nahi dut benetan eaj pse elkarrekin podemos

bakartxo tejeria andrea compañeros y compañeras

hizo el siguiente pronunciamiento el reglamento penitenciario prevé la excarcelación de los reclusos que se encuentren en situación de padecimiento y de grave enfermedad

amplios basados en la generosidad y en principios humanitarios es una demanda ampliamente respaldada por gran parte de esta sociedad tanto por instancias políticas como sociales sería deseable de cara al futuro una unificación de criterios que llevara a una aplicación normalizada y directa de esta medida por los juzgados de vigilancia penitenciaria

gesto por la paz mil novecientos noventa y seis qué pasa a qué se juega tuve hace unos años a un

veintiséis años en la cárcel lo tuve de paciente fito del casco viejo hepatopatía severa bilateral severa cardiopatía severa

la gente sale muy machacada de la cárcel veintiséis años veinticuatro veintisiete diecinueve

y se murió al de unos meses no murió en la cárcel cuántos presos

después de veinte años que no están en las estadísticas claro

es que duran mucho como nuestro ministro de interior dos meses

qué somos los médicos nosotros no vamos a colaborar ni las asociaciones en las que participamos

no vamos a participar en paripés por lo tanto el ministro de interior tiene que reflexionar sobre por qué

saca esta circular y utiliza palabras artificiales como patente estado

por qué porque tiene criterios de oportunismo político electoral

y porque no cumple la ley la ley internacional y la ley del estado español y además porque no sabe lo que es trabajar con criterios humanitarios lo que es trabajar con criterios científico técnicos para certificar acreditar y dar tratamiento continuado a enfermos crónicos para prevenir complicaciones no sabe y sus asesores o asesoras lo hacen mal elkarrekin podemos creemos

lo cual agradecemos y estamos encantados es y puede ser un elemento histórico en el parlamento vasco sé que se ha discutido muchas veces sé que colectivos militantes que están muchas veces sobre el tema puede ser muy interesante en el marco de la trasferencia de prisiones en el marco del momento político de cambio

creo que es muy importante que demos la importancia valga la redundancia debida a este acuerdo político que tiene que ver con la cultura de los derechos civiles con la cultura de los derechos humanos

señora presidenta decía el señor arzuaga y el señor uria

se quedaba solo pues mire si nos tenemos que quedar solos diciendo defendiendo que españa es un estado de derecho

que no es un estado en el que rija la venganza sino un estado cuyo derecho penal está inspirado en la justicia en la justicia y un derecho penal

como otros derechos penales si uno mira al derecho comparado de francia inglaterra los delitos hay que cumplirlos

cumplen sus penas en las cárceles que la cárcel es mala por supuesto pero que por justicia

tiene que cumplir la condena que las leyes le imponen por la comisión de ese delito eso no es un derecho penal vengativo eso es un derecho penal justo

existe un principio humanitario que dice que en determinadas condiciones cuando existen enfermedades tienen que ser atendidas porque el principio de humanidad y todos los presos tienen derecho a la salud porque porque estén internos no quieren decir que no gocen

por supuesto y eso rige en españa eso rige en nuestro estado de derecho y eso es lo más grave que hoy aquí

poner en duda y en solfa el estado de derecho y la verdad es que de algunos pues uno se lo espera más que de otros

mire si no fuera porque tratamos un tema tan serio sería para reiterar aquí

pero como es un tema tan serio no lo voy a utilizar porque de verdad

que usted hoy aquí se haya unido a esa imagen de que nuestro estado de derecho no es un estado garantista porque eso es lo que ha quedado sobre la mesa y eso eso es lo que fluye en esta enmienda transacción porque le exigen al gobierno de españa el cumplimiento

que ya lo está haciendo y obvian unos requisitos que lamento que usted no comparta y lo tengo aquí no comparta

en el congreso de los diputados cuando se trató este tema que decía claramente que cuando el artículo noventa y ocho del código penal exige para la excarcelación

esos son los requisitos usted aquí hoy va a firmar que obvia esos obvia esos requisitos insta al cumplimiento de una legislación como si no se cumpliese porque en la circular

hay posibilidad de revisión eso es lo que dice la circular

y no sea de bildu o de podemos pero desde luego bastante tranquila porque de leyes

bastante más que ustedes yo entiendo de algunos de verdad lamento no nos importa quedarnos solos en la defensa

de nuestro estado de derecho señora romero porque ustedes del partido socialista de euskadi de verdad creo que tienen un síndrome de estocolmo que

ya estén abducidos y hayan asumido el discurso nacionalista como lo hemos dicho en alguna ocasión aquí y en ese pacto bien claro se le ve es preocupante

en un tema como este de la calidad del estado de derecho de la calidad de nuestra legislación penitenciaria de que si existe o no existe el principio humanitario en nuestras leyes que asuman ese discurso de bildu ya no es que sea preocupante
es que es para hacérselo mirar nada más muchas gracias eskerrik asko llanos